gobernu kontseiluak aprobatutako testuan islatu zen debo decir que desde la elaboración del primer borrador del texto

con el propio tercer sector social para nosotros era irrenunciable lograr el consenso con sus representantes en la mesa de diálogo civil

hasta la aprobación de un proyecto de ley como todos conocemos son largos y son difíciles a veces como así sucedió con este caso hasta su aprobación en el consejo de gobierno permítanme ahorrarles el proceso del que tienen cumplida

importante es también significar que con posterioridad la labor realizada por las y los parlamentarios miembros de la ponencia ha enriquecido el texto

suficientemente en el primer proyecto con su aprobación no me cabe duda euskadi habrá ganado en participación de la sociedad en la programación ejecución y evaluación de las políticas sociales cuál es la pretensión de esta ley el gobierno pretende hacer

a través de esta recogiendo una amplia gama de disposiciones normativas que caminan en esa misma dirección

tiene que haber otras circunstancias y otros indicadores que lo identifiquen y finalmente es preciso deslindar al tercer sector social

del tercer sector como pueden ser el cultural

en la confección de la ley se ha puesto énfasis en esto en definir el tercer sector social acotar correctamente sus ámbitos de actuación

los límites de su interacción con la administración y con los servicios de responsabilidad pública por tanto esta ley

los valores en los que se tiene que sustentar darle presencia y establecer

sociales por parte de la administración pública y puesto que se consideran un valor importante fijar también las estrategias que la administración pública debe llevar a cabo para potenciar su presencia y sus situaciones

lantzeko con esta ley damos un paso importante en la consecución del tercer sector social que euskadi necesita un tercer sector que tiene que ser

que cuente con una base social amplia que mantenga un vínculo fuerte entre las organizaciones y personas que las integran que ofrezca empleo de calidad que sea sostenible y autónomo fortalecido y coherente transparente y reconocido

que estreche lazos si internamente y que además esté

la nueva norma no solo regulará la actividad de las organizaciones

sino también la de aquellas que lo hacen en otras esferas de las políticas sociales tales como el empleo el sistema de garantía de ingresos las familias

las principales aspectos y medidas que contempla el proyecto de ley son por un lado la definición normativa de lo que entendemos por tercer sector social en euskadi de todas

organizaciones de iniciativa social que realizan actividades en el ámbito de intervención social

y que se entiende como servicio y qué se entiende como servicios sociales de interés general definición asimismo del ámbito de la intervención social y por último

definición la definición de principios criterios instrumentos para la colaboración y cooperación del sector tercer sector social

entre otros aspectos se recogen por un lado la definición del principio de diálogo civil y la canalización de su ejercicio a través de la mesa de diálogo civil de euskadi en segundo lugar la participación del tercer sector en órganos consultivos de las administraciones públicas vascas

la definición del espacio de cooperación y colaboración entre el tercer sector y el sector público dentro del ámbito de la intervención social

por un lado la definición de una manera amplia y profunda del espacio de cooperación en relación a los sistemas de responsabilidad pública y también de los espacios de interacción entre sistemas contemplando tanto la cooperación en la gestión de estos sistemas y espacios

de los servicios de responsabilidad pública vinculados a los mismos así como en la función de referente y la coordinación de caso siempre dentro de los parámetros que se definen para cada uno de estos aspectos en el proyecto de ley y en la normativa de referencia que cada sistema a fin de garantizar

la definición de los requisitos para considerar que la actividad de una entidad tiene carácter singular tres la definición del espacio de colaboración en el desarrollo de otras actividades de interés general distintas a la provisión de servicios de responsabilidad pública

los instrumentos previstos para el desarrollo de dicha colaboración convenios y acuerdos marcos de colaboración y cooperación régimen especial de concierto convenios

de carácter singular se podrá formalizar también a través de convenios de conformidad con la ley de servicios sociales

la promoción del tercer sector social contemplando entre otros aspectos en primer lugar la puesta en marcha de una estrategia de promoción del tercer sector social de euskadi

en tercer lugar las medidas de apoyo al desarrollo de infraestructuras la realización de inversiones la mejora de la gestión y el impulso de la actividad económica de las organizaciones

en cuarto y último lugar el impulso del reconocimiento del tercer sector social de euskadi su contribución de su estructuración y de la colaboración

incluyendo la difusión de información básica sobre el tercer sector social en euskadi y su contribución una campaña anual de comunicación en torno a un día significativo

social de euskadi con el apoyo de las administraciones públicas vascas también se contempla en la ley y por último la creación del observatorio vasco del tercer

nuestro agradecimiento a todos por el trabajo realizado y manifestado que fruto de ese trabajo

sector social vasco cuyo impacto cualitativo en el campo social va a ser notable mucho mayor que el meramente económico que también es importante estamos ante un activo determinante para configurar una sociedad

más justa cohesionada y solidaria aspectos estos que presentan un gran valor añadido mila esker

sí muchas gracias presidenta buenos días señor

lehendakari en relación a esta cuestión creo que debe decirse en primer lugar algo que todos podemos compartir el buen trabajo que se ha llevado a cabo en la ponencia que pensamos ha mejorado el texto sustancial gracias a las aportaciones de los diferentesgrupos a través de sus enmiendas y a través de los debates llevados a cabo y también gracias a las aportaciones en forma de enmiendas y a los argumentos planteados por unión progreso

legal mejorado en relación a lo que se nos presentó por parte del gobierno upyd presentó sobre el texto inicial veinticuatro enmiendas parciales de las cuales

quedando vivas inicialmente nueve que sometemos a votación en su momento en la comisión finalmente una fue retirada con lo cual quedarían ocho vivas que mantenemos hemos mantenido las enmiendas para este

y otras como la ciento diecisiete en la que proponemos la supresión del artículo dos punto tres por diferencias radicales con el planteamiento

del tercer sector no puede ser o suponer una especie de coladero para todas las organizaciones preexistentes es cierto que muchas de estas organizaciones pueden

para ello presentábamos y proponíamos una enmienda en la que quedaba incluida una disposición transitoria que daba la oportunidad a estas organizaciones de reestructurarse para poder cumplir con los requisitos que a nuestro juicio deberían ser necesarios para poder formar parte del tercer sector social

en nuestra opinión estas organizaciones recogidas en el artículo dos punto tres deberían redefinirse y adaptarse al sistema para que todas las organizaciones del tercer sector puedan actuar bajo las mismas condiciones y cumpliendo todos los requisitos de cualquier manera consideramos que se ha mejorado este apartado al acotar el tiempo

incluidas como parte del tercer sector y en el caso del apartado b también se ha mejorado intentando reforzar el carácter no lucrativo de las mismas otra de las enmiendas en las que consideramos que se reflejaba otro de nuestros planteamientos de mayor calado es la enmienda ciento dieciocho al artículo hirua con la que reforzar la figura del voluntariado y eliminar ese tipo de organizaciones que subsisten digamos con el único fin con el único objetivo de mantener a sus trabajadores

al menos el cincuenta por ciento de las personas que trabajan para la organización sean voluntarias también tenemos otras enmiendas con un contenido de menor peso pero que

se trataba de reforzar la existencia de personalidad jurídica propia tomando como base la legislación nacional también mantenemos la enmienda ciento veintiséis al artículo diezbatc y la enmienda número ciento veintinueve

consideramos que la figura del coordinador de caso ya está recogida en la ley doce barra dos mil ocho de cinco de diciembre de servicios sociales y por tanto

innecesario que sea nuevamente recogida en esta ley

enmienda pretendemos garantizar que se articule mejor la participación de las administraciones públicas vascas la enmienda ciento treinta y cinco el artículo veinte punto uno con la que queríamos cambiar podrán por deberán esta modificación

también ha sucedido de manera muy parecida en el artículo

por este cambio introducido pero con esta enmienda también pretendíamos eliminar el trato de favor a las cajas y a las fundaciones bancarias lo que finalmente no se ha visto

y finalmente la enmienda ciento treinta y siete que recoge una disposición adicional tercera esta enmienda es muy entender aquí se plantea un plazo de un año para que el gobierno establezca la estrategia del tercer sector en euskadi es lo que finalmente queda recogido en la ley que el gobierno

un año desde la aprobación de la ley para presentar una estrategia nos parece que es demasiado tiempo y lo que planteamos con nuestra enmienda es que sean seis meses el tiempo que

bastante razonable y entendible nos parece mucho un año por lo tanto proponemos que se reduzca este tiempo a seis meses en cualquier caso como he dicho al inicio consideramos que el resultado final aunque mejorable es bueno

fruto del diálogo entre todos los partidos políticos entre todos los grupos de la cámara y por tanto nos mostramos bastante satisfechos

por lo que finalmente votaremos a favor de esta ley nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

buenos días gracias presidenta lehendakari consejero señorías estamos en el trámite final de un proyecto de ley que hemos trabajado yo entiendo que

el diecisiete de septiembre pasado comenzamos con las comparecencias pasamos al trámite de enmiendas alguna ampliación

necesaria para el trabajo de los grupos parlamentarios a los trabajos de la ponencia con cinco o seis reuniones con tranquilidad con debate con análisis al trámite anterior

y a este pleno y eso en una ley que no era una ley contenciosa con acuerdo del sector

y con una actitud además proactiva de los grupos de la oposición esto es para que vean ustedes cómo se pueden aprobar proyectos de ley que se han presentado dos semanas anteriores o los que vienen con más discrepancia con más carga política con más complejidad jurídica estas reflexiones para que sus señorías vean el panorama que se avecina en estos dos meses de prisas

bien entrando en materia lógicamente el objeto de este proyecto de ley es regular las entidades del tercer sector social

hacer que se refuerce su capacidad como interlocutores ante la administración de la comunidad autónoma vasca respecto de las políticas públicas sociales y definir las medidas de fomento que los poderes públicos podrán adoptar en su desarrollo y beneficio es decir

organizaciones iniciativas y sus correspondientes asociaciones redes fundaciones federaciones de carácter privado

bajo diferentes modalidades y que responden a criterios de solidaridad y de participación social con fines de interés general y ausencia de ánimo de lucro impulsan el reconocimiento de los derechos civiles así como de los derechos económicos sociales culturales de las personas y grupos que sufren condiciones de vulnerabilidad o que se encuentran en riesgo de exclusión social

desde luego pedida por este sector y que también ha sido regulada en otras en diferentes instituciones políticas nuestras enmiendas fueron cincuenta trataban de no modificar el fondo de la ley sino de hacer la ley más sencilla algo menos farragosa menos reiterativa de lo que es nuestras enmiendas han pretendido mejorar la comprensión de esta ley está claro que más por una cuestión de forma que de fondo pretendíamos

a la vista de la ley que recientemente el congreso de los diputados sobre tercer sector de acción social también una ley muy bien venida por el sector

han sido aceptadas que han formado parte de la transacción

retirado más de diez enmiendas también en todo este transcurso a la vista de los acuerdos de los debates en ponencia o de las enmiendas de otros grupos parlamentarios o sea que básicamente tenemos un grueso de enmiendas pero vuelvo a decir que forman parte

forman parte de lo que nosotros entendíamos que era hacer una ley pues un poco más sencilla un poco menos reiterativa

es lo que cuenta y es donde estamos de acuerdo parece que en términos generales

están de acuerdo con el trabajo realizado y entendemos que todo lo que sea esa cuestión importante que es engrasar la relación entre la sociedad civil entre esa iniciativa privada iniciativa ciudadana con ese engranaje complejo a veces duro de la administración es bueno y más en cuestiones que tienen que ver con esencialmente con políticas sociales de asistencia social de intervención social de provisión de servicios sociales

de esta relación público privada que se va a consagrar con esta ley estamos hablando de una relación

básico pero también basada en la solidaridad y en la

de servicios vuelvo a decir fundamentalmente sociales aunque la lectura y de la regulación de la ley no solamente lo social o los servicios o la provisión de servicios sociales entra dentro del ámbito de la actividad que vayan a realizar esas organizaciones que son llamadas por esta ley o sea una ley que tiene que estar en conexión

ya se ha dicho también normativas importantes como la de servicios sociales y también con la búsqueda de una provisión de servicios que tenga unas características que tenga garantías pero que tenga las características de la calidad es decir que ese tercer sector y esas organizaciones esas entidades esas iniciativas privadas o esas federaciones redes

controladas y por eso la ley busca la garantía busca sus obligaciones busca los derechos de esas organizaciones

de cuestiones importantes a la hora de fijar que

de calidad y sea con garantías y nosotros además partiendo de la base de que tenemos unas entidades unas iniciativas de tercer sector social que está verdaderamente fortalecida

un tercer sector social fuerte un tercer sector social entendemos que muy preparado y que

en relación con las necesidades que todos vemos para afrontar eso esa responsabilidad pública

es decir hay una fase de la ley que también es importante

resume en dos palabras es la cooperación y la colaboración en la intervención social

no de imposición no de obligación es una cuestión de fundamentalmente de cooperación y de colaboración de actuar en las políticas de gestión

en los sistemas de responsabilidad pública es decir una colaboración y una cooperación público privada sana siempre hay un miedo a veces a la colaboración público privada en materias de provisión pública

colaboración público privada sana y además perfectamente encaminada a importantes

desde mi grupo siempre defenderemos una colaboración público privada en materias esenciales para esta sociedad eso está dentro de nuestro ideario y desde luego

en esta ley se refleja y lo que es importante también para finalizar las medidas de fomento

estas entidades pero desde luego que hay que pensar en cómo fomentar su actividad en cómo darles cauce de actuación facilitarles el trabajo y entendemos que de la misma manera que la ley recientemente aprobada en el congreso de los diputados del tercer sector de acción social con la

el llamado capítulo de promoción del tercer sector social

donde entendemos que hay importantes medidas que también pueden ser utilizadas por las asociaciones y entidades del tercer sector social pero también que van a facilitar a la administración la realización de sus políticas públicas en materia de servicios propios de esta ley

que se da un paso también importante en lo que la definición de la promoción de las

social es decir para finalizar que salvo por coherencia con alguna de las enmiendas mantenidas en la que nos abstendremos en alguno de los de los artículos de la ley que entendíamos mejor definidas

desde luego que votaremos a favor de la ley muchas gracias eskerrik asko barrio jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria

egun on lehendakari consejero hoy hablamos del tercer sector

en principio lo importante es darle valor a su trabajo

por cierto veo a personas que han trabajado conmigo nunca creí que vendría a este parlamento

de una ley tan importante para el tercer sector social por eso quiero empezar diciendo que el tercer sector social es un activo fundamental para avanzar en una sociedad como la nuestra en la que tiene que ser más justa más solidaria más cohesionada participativa y democrática

pero especialmente en la que estamos viviendo estos últimos años hay un incremento considerable de la tasa de pobreza y desigualdad social es verdad que estamos mejor que otras comunidades autónomas pero estamos peor que otras regiones a nivel europeo por lo tanto tenemos que seguir todos trabajando de la mano y avanzando hacia

que constituyen el tercer sector suelen agruparse en federaciones porque

en federaciones que aunque bien es de distintos territorios te unes en una federación con un objetivo común y también

y se dedican a promocionar la solidaridad la participación social la inclusión y la cohesión social de ellas penden muchas personas

y además unas ciento cincuenta mil personas voluntarias que trabajan

y este aspecto hay que remarcarlo porque el trabajo del tercer sector se revierte también en la sociedad y supone un ahorro económico en muchos ámbitos de la vida también por ejemplo en el sanitario porque trabajar con las personas con dependencia con discapacidad es muy importante para que tengan una vida normalizada

y yo entiendo que esto hay que ponerlo en valor y el gobierno tiene que saber que es así y me consta que lo saben los socialistas vascos expresamos nuestro reconocimiento a esa labor que realizan

y personas que lo componen y entendemos que este proyecto de ley significa mucho para todas ellas porque establece un marco jurídico que regula su actividad

y contempla que la participación en esa mesa de diálogo civil

y en el consejo económico y social el anteproyecto de la ley del tercer sector social

en febrero del dos mil quince comparecieron en la comisión de empleo y políticas sociales el consejero señor toña representantes de sareen sarea red del tercer sector de euskadi y de la mesa de diálogo civil representantes

de personas con discapacidad física orgánica del país vasco también fernando fantova representantes del sindicato lab y de la diputación foral guipuzcoana algunos de los cuales están presentes hoy en este parlamento agradecerles sus aportaciones y también quiero agradecer todas las aportaciones que nos han ido llegando a través del correo electrónico fruto de todo este trabajo los socialistas vascos

diecisiete han sido incorporadas tal cual doce han sido transadas hemos retirado para dar cabida a las enmiendas de otros grupos no ha quedado ninguna enmienda socialista reservada porque han sido prácticamente todas

como tónica general nuestras enmiendas han ido dirigidas a incorporar términos y aspectos que el anteproyecto no contemplaba clarificando y aportando mejor redacción en la exposición de motivos hemos incorporado términos muy importantes que definen al tercer sector como el hecho de que son

como el hecho de que son estructuras legales inscritas en los registros correspondientes a su figura jurídica de acción voluntaria no lucrativas privadas y además de autogobernadas autogestionadas esto es también muy importante hemos incorporado colectivos con los que

además de con personas mayores mujeres personas con discapacidad las personas afectadas por una enfermedad las personas inmigrantes y las personas en situación de desempleo hemos querido incorporar a la infancia a la adolescencia a la juventud las personas

violencia machista esto también lo ha incorporado otro grupo personas con dependencia o las personas en situación de riesgo

y por supuesto también la ley todas las personas en general además del término conciliación hemos también añadido algo que es muy importante y que tenemos que barajar y empezar a poner todos en nuestro manual de diálogo que es la corresponsabilidad tan importante para alcanzar la igualdad en la sociedad vasca en referencia al articulado y como hecho curioso quiero destacar que en el transcurso de la ponencia uno de los artículos que más enmiendas recogió fue el número seis que corresponde a los principios de actuación

dos del grupo eh bildu y cuatro del grupo socialistas vascos y logramos consensuar entre los tres grupos un texto transaccional que incorporamos al proyecto de ley pero finalmente

de ley de principios que es muy importante los socialistas vascos hemos rescatado con voto particular el texto del artículo del informe de la ponencia y lo hemos hecho por coherencia

donde quisimos eliminar a las empresas lucrativas de ese artículo porque no tiene ningún sentido incluirlas en una ley

esos principios hablan de participación social esos principios hablan de solidaridad y justicia

y corresponsabilidad en la inclusión social hablan de diálogo civil y democracia participativa hablan de cooperación entre el sector público y la iniciativa social y hablan de transversalidad de las actuaciones orientadas a la inclusión social de todo eso habla ese artículo seis por eso entiendo que

de nuevo a ser integrado en este proyecto de ley que hoy debatimos en el artículo diecisiete referente a la estrategia de promoción del tercer sector social de euskadi

del tercer sector pero también hemos añadido también a las organizaciones en general porque hay organizaciones que de momento no están integradas en esas redes y tienen que tener

una conexión con el propio gobierno y que a través de la mesa de diálogo civil de euskadi se elabore una estrategia de promoción del tercer sector social y el grupo socialista también

que impulsarán cada una de las partes y actuaciones en colaboración así también como esos mecanismos de coordinación que se tienen que establecer a tal fin tan importante

acciones y medidas de fomento del tercer sector social de euskadi que el gobierno vasco

sus diferentes departamentos tanto en el ámbito de intervención social como en relación con la promoción de la actividad económica y de las organizaciones que la desarrollen nosotros hemos añadido

relacionarán las subvenciones y ayudas en el departamento competente

promoverá a fin de facilitar el funcionamiento de las organizaciones y las redes del tercer sector social así como la realización de las actividades sociales de interés general

organizaciones y las redes y bueno como última aportación y creo que entiendo que no ha habido ningún problema agradecemos a todos los grupos el buen clima que ha habido y el buen el recibimiento también con un artículo nuevo que planteaba el grupo socialistas vascos

previa consulta en la propia ponencia a los comparecientes y a las comparecientes que ahí estuvieron en la posibilidad de incluir el observatorio vasco del tercer sector y bueno pues esta ley lo ha incluido los socialistas presentamos este artículo nuevo que ha sido

en su totalidad solo ha habido un cambio técnico de lenguaje y bueno lo que hemos aprobado es que esta dependerá del gobierno vasco que será competente en materia de servicios sociales y bueno que será un instrumento técnico de la administración general de la comunidad autónoma del país vasco encargado de la recopilación sistematización actualización

y redes integradas en él asimismo con carácter bienal

amplio e integral sobre la situación y evolución de esta parte de la realidad social

diversidad funcional que se elevará a la mesa de diálogo civil u organismo que lo sustituya y en último lugar en el desarrollo de sus atribuciones el observatorio vasco del tercer sector social

sector social y reglamentariamente se establecerán las normas precisas sobre sus competencias tareas y funcionamiento hemos logrado mejorar el anteproyecto de ley original esto no hubiera sido posible sin el buen clima que se ha desarrollado la ponencia

parlamentarios y por supuesto agradecer el trabajo de las organizaciones y redes del tercer sector social eskerrikasko eskerrik asko sarasua andrea

hirugarren sektore sozial zabala dagoela gure erkidegoan esta primera realidad la realidad de estas organizaciones que trabajan por la cohesión y la inclusión social y por evitar que haya colectivos que puedan quedar excluidos de unos niveles mínimos de bienestar

y el reconocimiento y ejercicio efectivo de los derechos sociales políticos y económicos con especial atención a quienes afrontan situaciones de vulnerabilidad y exclusión desprotección o dependencia

entendiendo por tales los servicios sociales la promoción de acceso al empleo y cualquier otra orientada a promover la inclusión social incluidas las actividades desarrolladas con esta

entre ámbitos políticas y sistemas entre otros los espacios sociolaboral sociohabitacional socioeducativo sociosanitario sociojudicial

una primera realidad en la que podemos observar unos clarificadores datos el tercer sector social en euskadi está conformado

entidades con una plantilla que ronda las treinta y cinco mil trabajadoras y trabajadores

tiene un impacto en la economía superior al dos por ciento de nuestro pib

podemos afirmar que su impacto en el campo social es muchísimo mayor es un activo determinante en configurar una sociedad más justa solidaria

un importante valor añadido nos parece interesante destacar dentro de esta primera realidad dos detalles dos detalles esenciales del tercer sector en nuestra comunidad la forma de organizarse y la forma de canalizar la interacción con las instituciones estoy hablando de dos instrumentos clave

saren sarea trece redes que aglutinan a numerosas organizaciones que tiene como misión la promoción de una sociedad cohesionada inclusiva y participativa al tiempo que trabaja por la consolidación y el reconocimiento del propio

y la mesa de diálogo civil el instrumento que posibilita el diálogo entre el sector y la administración máximo órgano de consulta y participación del tercer sector

erakundeekin komunikatzen da baina ez da gure ordenamenduan islatzen una segunda realidad esta no deseada

nos recordaba el sailburu toña en su discurso a su antecesor el sailburu aburto quien en una de sus primeras comparecencias en febrero del trece nos trasladaba

y le cito proponer la elaboración en esta legislatura de una ley sobre el tercer sector ley que dé valor a todas estas entidades que prestan servicios a la ciudadanía y que regula y que regule la ley su marco de relación con la administración

y en febrero del quince el ejecutivo aprueba el proyecto de ley un sailburu otro sailburu un gobierno un programa un modelo de sociedad

y siete del segundo de los compromisos para una euskadi más solidaria con las personas más desfavorecidas dentro del programa electoral que el partido nacionalista vasco sometió a la consideración de la ciudadanía en octubre del doce donde planteábamos compromisos claves como el impulso de nuevos modelos de gestión

los nuevos canales de comunicación entre los distintos agentes el avance en el modelo mixto de colaboración la atención al tercer sector social como modelo de gestión genuino de un sistema de responsabilidad pública cumpliendo así un compromiso con nuestra sociedad y qué persigue esta ley cuáles son sus objetivos

en segundo la concreción del diálogo civil en tercero la participación del tercer sector en la gestión de los servicios de responsabilidad pública y por último y con carácter general las estrategias de promoción del tercer sector social

es dotar al sector de un marco legal que lo defina se le da nombre jurídico lo que posibilita que sea sujeto y protagonista de las políticas sociales se les da visibilidad como nos recordaban en sus comparecencias se define el sector sus fines y sus organizaciones

la ley supone el reconocimiento efectivo a la importante contribución social que conlleva su labor son activo fundamental en la construcción de una sociedad cohesionada y así se les reconoce como nos acaba de comentar el sailburu la nueva norma no solo regulará la actividad de las organizaciones que trabajan

sino también la de aquellas que lo hacen en otras esferas de las políticas sociales esto es algo que nos diferencia de la ley que se aprobó en el congreso la cual

el gobierno ha ido de su mano juntos han ido de la mano han trabajado durante más de dos años en sus comparecencias nos hablaban de alta sintonía con el ejecutivo

y aquel trabajo previo que hicieron es lo que también ha impulsado el trabajo en esta cámara eta hirugarren errealitatea

legebiltzarreko lana ya modo de rápido cuaderno de bitácora recogiendo

el inicio el proyecto de ley marzo del quince el prometedor y rápido inicio con los escritos de solicitudes y de comparecencias

lo que se nos trasladó en general en esas comparecencias consenso previo

de la ley a la mayor brevedad y de repente la desesperante calma chicha en el plazo de presentación de enmiendas octubre primeros de noviembre finales de noviembre finales de diciembre un lento sinsentido y por fin casi con olentzero las enmiendas dos datos ciento treinta y nueve enmiendas sin contar dos enmiendas técnicas solo dos artículos el catorce del diecinueve sin enmendar esto podría darnos una inicial imagen

pero no es así y si se analizan los textos de las enmiendas con detenimiento llegamos rápidamente a una clara conclusión

lógicamente cada grupo desde su óptica la ponencia solo nos quedaba aplicarnos

todos en cada una de las sesiones y así se ha hecho utilizando también los tiempos entre sesiones para intercambiar textos buscando siempre el acuerdo y cuál ha sido el resultado que hemos ido consiguiendo acuerdos así de fácil querer y hacer

algo menos del veinte por ciento retiradas al quedarse en gran medida sin sentido ante las transacciones y solo un treinta por ciento rechazadas acuerdos

perseguirlos conseguirlos desde aquí nuestro más sincero reconocimiento al trabajo de todos y cada uno de los grupos parlamentarios eskerrik asko denoi

favor la ciento treinta y siete y la ciento treinta y nueve aparte

bai bai bai bai pero pueden votar diferente

zuenak dira son uno seis siete y ocho son vuestras enmiendas

la seis aparte eso es pero pueden votar ellos

bai maneiro jauna sí cuáles son los artículos por favor que propone

son artículos que han sido enmendados por diferentes grupos entonces yo pido la votación separada bai bai votación separada de esos artículos por favor

sí gracias hamabi haber eh las vuestras o sea que aquí

gracias señora presidenta egun on guztioi isiltasuna mesedez gracias señora presidenta bien hace

una interpelación al lehendakari sobre cuál era exactamente el compromiso que el gobierno vasco que él preside tenía con las líneas cuatro y cinco del metro

cuyo desarrollo iba en el programa electoral con el que se presentó a las elecciones pero que quedó ahí en el programa electoral y después de la contestación de la señora consejera el otro día parece que va a quedar ahí por bastante tiempo porque aquí las inversiones se planifican

y sosiego todos algunos sobre todo y solo en campaña electoral apostamos por el fomento del transporte público y sostenible como indicador de progreso y de desarrollo todos por tanto apostamos por impulsar el metro como un símbolo de ese progreso y de ese

y es que es así las ciudades más modernas las principales ciudades europeas disponen de redes de ley de metro muy amplias lo dijimos entonces y lo queremos volver a destacar alguna

un elemento de vertebración de bilbao de bizkaia y por tanto de euskadi

en otras partes de españa ciudades como madrid y barcelona cuentan con redes de metro que conectan todo el territorio y las ampliaciones de esta redes en esas ciudades

construyendo kilómetros de metro aquí no hemos casi ni despegado

de prioridades de unos y otros en euskadi se nos llena la boca hablando de progreso de desarrollo de evolución pero en algunas cuestiones como esta eso no tiene reflejo

tenemos que ofrecer una red de transporte que nos vaya acercando a esos parámetros de las principales ciudades europeas y del resto de españa es necesario que esa expansión del metro continúe que no se detenga y que se haga esa expansión

y no a ritmo de tren de mercancías como se hace ahora y dentro de esa red las líneas cuatro y cinco del metro son fundamentales como todos ustedes saben señorías

hasta el hospital de usansolo por ello las dos líneas tienen un área de influencia importante que afecta a miles de vizcaínos por tanto a miles de vascos

que sustenta al gobierno por ello en el programa del partido nacionalista vasco en las pasadas elecciones se recogía ese desarrollo de las líneas cuatro y cinco del metro se recogía como uno

porque a pesar de llevarlo en el programa poco después de ganar las elecciones ese compromiso se diluye y se dice

que esas líneas no van a comenzarse en esta legislatura le preguntaba entonces qué significa exactamente para el pnv el desarrollo de las líneas cuatro y cinco porque no ha pasado

cuál es el compromiso que este gobierno tiene con esas líneas o mejor dicho cuál es el que va a tener porque en esta legislatura desde luego no ha tenido ninguno y el señor urkullu ni siquiera contestó hoy ni tan siquiera está aquí presente parece que lehendakari sí sale a contestar cuando se le pregunta

pero cuando se trata de dar cuenta de la gestión quizás por el paupérrimo balance que tienen que ofrecer a esta cámara y a los vascos no sale nunca

y nos contestó la señora consejera que tampoco está hoy aquí el tema tampoco le interesa bueno lo de contestar es un decir porque el otro día

nos habló de diversas actuaciones en la línea uno y dos del metro nos habló de la línea tres que por cierto también lleva retraso porque esta línea tenía previsto su finalización en el dos mil trece

reorientarla para adoptar los ritmos a la disponibilidad de los recursos existentes y se nos dijo que esa línea

y qué sucede hay que preguntarse que son incompatibles son incompatibles ahora pero no lo eran en el dos mil nueve cuando gobernaba el partido socialista

pues bien tengo que decir que esos proyectos llevan años definido

que aquí se expusieron y tal y como aquí se expusieron

exactamente como digo las estaciones y con las descripciones que la consejera

se establecían las estaciones y por cierto se fiaba su terminación para el año dos mil dieciséis este año y qué tenemos nada más que papel

en el año dos mil once en un estudio del propio metro para las actuaciones hasta dos mil veinte

se encontraba en estudio informativo y la previsión era que estuviese en funcionamiento en el dos mil dieciocho la cinco como digo que llega hasta el hospital de galdakao de usansolo concretamente se esperaba que fuese en dos mil dieciséis en ese momento

y se exigía y digo bien se exigía que se incluyesen fondos en los presupuestos del año dos mil doce para esta línea y que su construcción se iniciase ese mismo año

y al contrario de lo que pudiera pensarse el gobierno vasco de nuevo en manos nacionalistas anuncia en el dos mil catorce que en los tres años siguientes no tiene previsto impulsar las líneas cuatro y cinco del metro y ello es corroborado

es decir en las juntas generales la que va hasta el dos mil diecinueve la línea cinco tendrá que esperar

supedita la construcción de estas líneas a la evolución de la recaudación así lo dijo

cuando dijo que se espera conocer esa recaudación para que de acuerdo con el gobierno vasco se establezcan los plazos y las prioridades y la propia consejera señaló que se está mirando al futuro pero eso sí planificando a largo plazo como digo con calma

y por ello nos tenemos que preguntar por qué si se está en la oposición tiene que ser para ya para el año siguiente y en cambio cuando se está en el gobierno

por qué es una prioridad estas líneas cuando no se está en el gobierno pero sí

por qué unas líneas demandan apasionadamente con exigencias hace cinco años

para establecer los plazos y las prioridades por qué la llegada al gobierno supone una inyección de valeriana que trae la calma y el sosiego a la construcción como décimos cuánto hay que esperar y qué significa el desarrollo de las líneas cuatro y cinco del metro de bilbao creemos que una inversión tan importante

seriedad y rigor requiere establecer un cronograma requiere establecer unos plazos siquiera de inicio de la construcción y requiere un plan económico y en esta legislatura no ha existido absolutamente nada absolutamente nada de esto parece claro que los proyectos de construcción de las líneas cuatro y cinco del metro de bilbao son un recurso electoral

recurrente del partido nacionalista vasco pero que desde luego no son ni un compromiso político ni un compromiso económico por parte de las instituciones en las que gobierna

que en estas elecciones en las próximas elecciones autonómicas volverán

a prometer la línea cuatro y cinco del metro como dije y vuelvo a repetir hoy ahora no ha habido ni un solo candidato

que no diga que estos proyectos son prioritarios pero lo que hace es eso

pero no llevarlo nunca a la práctica ya sabemos que a estas alturas los vecinos de bilbao de errekalde de matiko y de galdakao tienen que seguir

en el parque desde luego no la estación de metro o sino en la lanzadera

es la gestión de este gobierno esto es la gestión del señor lehendakari decir lo que se ha hecho es gestión no actos

eso no es hacer balance de gestión es venir aquí y rendir cuentas de lo que han prometido y de lo que no han hecho en este caso

ni salió a contestarnos como digo ni tansiquiera hoy está aquí y tienen que dar las explicaciones en la ciudadanía porque a ver si lo que vale

para ustedes no vale para los demás porque el pnv exige siempre a los demás lo que no se exige a sí mismo y tienen que decir claramente que no ha cumplido los compromisos en numerosas ocasiones sin embargo cargan contra otras administraciones

contra la administración central y su falta de compromiso la supuesta falta de compromisos con las infraestructuras vascas como lo han hecho

las trabas políticas que ha habido saben las dificultades económicas que ha habido con un gobierno que ha pasado por muchas más dificultades económicas que el propio gobierno vasco y que sin embargo

no se han comprometido con el transporte en euskadi reclaman a otros compromiso mientras que

no ofrece ninguno porque las líneas cuatro y cinco del metro duermen en el cajón de las promesas electorales de los candidatos del pnv y de ese cajón lo volverán a sacar ustedes en campaña electoral quedaron a finales de mayo y

seguramente otra vez en las próximas elecciones como digo a algunos se les llena la boca para criticar a madrid pero esconden la cabeza porque no quieren dar cuentas de sus propias responsabilidades y compromisos porque las han incumplido totalmente

pasar de las promesas electorales que hace falta dejar de vender humo que hay que dar cuenta de la gestión y hay que utilizar los instrumentos que el autogobierno nos da

y desde luego mejorar el transporte es mejorar ostensiblemente la calidad de vida de los vascos pero como dijo el diputado foral

y está claro que para ustedes no es una prioridad las líneas cuatro y cinco no son una prioridad y por eso en cambio etb sí

cuáles van a ser las cantidades que el gobierno vasco se compromete a darles pero son incapaces de decir cuáles son las cantidades de aquí a cuatro años se comprometerían ustedes y este gobierno

fuesen realidad no son incapaces lo han sido incapaces en esta legislatura y son incapaces nosotros creemos que los vascos se merecen se merecen saber cuáles son los plazos previstos cuál es el cronograma de actuaciones y cuáles son los compromisos presupuestarios que esta cámara está dispuesto a hacer para que esas líneas cuatro y cinco sean una realidad y eso es lo que le solicité al lehendakari en este parlamento

ni tan siquiera manejan plazos de inicios de las obras de finalización de las obras

cada una de esas estaciones ni tan siquiera eso tiene previsto el gobierno vasco y si lo tiene previsto por qué no contesta cuál es la razón para no

contestar y no obtuvimos ninguna respuesta porque lo que hizo la señora oregi se puede llamar todo menos respuesta todo menos respuesta

sucintamente esas fueron sus palabras sucintamente las líneas y nos dijo que si queríamos conocer con más detalle los proyectos que estábamos invitados a hacerlo

infinitamente más que nos invitara a poner la primera piedra que nos invitara a las obras al inicio de las obras

es que los vecinos de bilbao los vecinos de rekalde de matiko los vecinos de galdakao le agradecerían infinitamente más

y no que les inviten a ver el proyecto porque para eso como dije hace quince días ya tienen wikipedia pero yo creo que los vecinos están hartos

en un buscador solo veas el dibujo y que el gobierno vasco con el lehendakari a la cabeza

eso sí en campaña electoral volverá a decir que es una prioridad harán ustedes un acto verdad en la plaza de rekalde y volverán a decir que es una prioridad irán ustedes a galdakao a la plaza roja

pues será a partir de ahora porque hasta ahora no lo ha sido en absoluto ya lo digo dos mil dieciséis este año estaba previsto y no hay puesto ni una piedra

un proyecto que lleva desde el año dos mil nueve hecho dibujado y en el otro caso desde antes pero sobre todo con el detalle que dijo la señora oregi desde el dos mil once y qué hay humo

ni un compromiso y eso es lo que nosotros queremos arrancar hoy aquí porque creemos que los ciudadanos se merecen los compromisos en todo momento
no solo en campaña electoral nada más muchas gracias eskerrik asko

adarra jotzen ari gatzaiela y de esto sabemos los socialistas porque fue el anterior gobierno

a pesar de vivir el peor momento de la crisis cuando peores eran los datos de ingresos y cuando con más deslealtad y crítica se comportó el entonces

no hubo excusas para comenzar las obras de la línea tercera que será una realidad dentro de unos pocos meses no hubo excusas para recuperar el pulso del desarrollo del tren de alta velocidad utilizando el autogobierno el que permite la y el descuento vía cupo para dejar en marcha todos los tramos de gipuzkoa no hubo excusas para comenzar el desarrollo de una solución en donostialdea que si no hubiera sido por la obstinación de eh bildu no estaría todavía

culminar insisto en plena época de crisis esto es lo que los socialistas damos cuenta sin excusas sin las excusas a las que el actual gobierno

porque simplemente es un gobierno con dificultades para establecer prioridades así en noviembre de dos mil catorce por sorpresa

el impulso de las líneas cuatro y cinco del metro bilbao que era

planificado en el desarrollo del transporte sostenible en bizkaia de hecho la propia señora

llegó a decir que las extensiones a rekalde y galdakao que es de lo que estamos hablando no

no sabemos si ahora son prioritarias los socialistas ya nos encargamos de denunciar este hecho pero no nos quedamos ahí hicimos algo más importante nos mojamos en este parlamento no nos quedamos de perfil como suelen hacer otros

estos proyectos presupuestando exactamente cero euros nosotros el partido socialista incorporamos en las cuentas una partida un millón setecientos treinta mil euros

para realizar los estudios de construcción aun sin realizar para esas líneas digo que nos mojamos no nos pusimos de perfil como hacen otros

fasean gaude sí que vamos a dejarnos de brindis al sol vamos a ver si aunque sea tarde este gobierno termina

y deja de esconderse tras la larga sombra del cumplimiento de las reglas del déficit pues claro que hay que ser responsable en el gasto

nadie duda de que la coyuntura económica no es la más apropiada para comenzar a las bravas grandes proyectos de infraestructuras es cuestión de prioridades pero la coyuntura económica no puede paralizar proyectos de futuro que es algo en donde está este gobierno hay que priorizar hay que pasar a limpio qué es lo que queremos hacer cuánto y cuáles son las perspectivas para poder pagarlo hauxe da

el metro de bilbao fue y es una apuesta estratégica por un

hoy en día y remarco lo de hoy en día parece no ponerlo en duda nadie pero para llegar al día de hoy hay que analizar su origen el origen de esa apuesta estratégica y también poner en valor el importante esfuerzo realizado y los resultados obtenidos hasta ahora así al origen conviene recordar que únicamente el partido nacionalista vasco y el partido socialista apostaron claramente por esta infraestructura en la década de los ochenta sí

por esta infraestructura que hoy todos alabamos y en lo relativo al esfuerzo realizado y los resultados obtenidos

y son muy importantes la deuda actual de las líneas uno y dos a la que los vascos y vascas

asciende a cuatrocientos cincuenta y dos millónes de euros y la línea tres donde se están concentrando los esfuerzos inversores actuales

a comienzos del próximo año va a requerir una inversión de doscientos setenta y nueve millónes de euros además están en curso los estudios y proyectos técnicos de las líneas cuatro y cinco al que se refiere la moción del grupo popular dicha moción propone instar al gobierno vasco a que antes de que finalice el actual periodo de sesiones

presente los plazos de inicio y finalización de las líneas cuatro y cinco del metro de bilbao así como el plan presupuestario correspondiente el otro día decía usted su capacidad de sorpresa

a nosotros también nos sorprende que una parlamentaria como usted y un partido como el suyo que se consideran serios pues haga una propuesta de este tipo entendemos que obedece a un puro electoralista y le vamos a contestar a los puntos que plantea en su moción

es totalmente inviable para un gobierno responsable y serio establecer en un mes un calendario un cronograma con plazos de inicio y finalización sin tener todavía los trabajos y los estudios técnicos terminados y los estudios constructivos de unos tramos de estas líneas

esperar a terminar los trabajos y estudios técnicos y ver la evolución de la recaudación sí ver la evolución de la recaudación para conocer la disponibilidad presupuestaria

en boca de algunos dirigentes del partido popular afirmaciones que van en esta línea en tercer lugar entendemos que tal y como lo plantea no es una decisión unilateral del gobierno vasco establecer ese cronograma como bien sabe esta es una

de bilbao se financian a través de la sociedad pública ets en el cual se financia el cincuenta por ciento entre el gobierno vasco

un acuerdo y también hay que ver respecto a la diputación foral de bizkaia cuáles son sus disponibilidades económicas y sus prioridades como bien decía y finalmente el tiempo estamos a un mes de finalizar el último periodo de sesiones de esta legislatura y plantear esto pues como décimos y también lo decía el portavoz del partido socialista nos parece precipitado y claramente dejamos

el que decida en base a datos técnicos y definitivos habla también la señora llanos del programa electoral del pnv al que se presentó en las elecciones del dos mil doce donde sí que es cierto que recoge como uno de los compromisos

metropolitano e interurbano y más concretamente respecto a este tema al metro de bilbao la iniciativa veinte del compromiso séptimo menciona la integración urbana del metro en urduliz

cuatro y cinco y a los hechos nos remitimos durante esta legislatura se han centrado los esfuerzos económicos principalmente en la finalización de los trabajos de la línea tres para que entre en funcionamiento a comienzos del próximo año con una inversión total de doscientos setenta y nueve millónes de euros aquí en esta cámara aprobamos una pnl

inaugurase antes de finalizar el dos mil dieciséis lógicamente estas obras como usted sabe no son matemática pura

parece razonable y todo ello sin olvidar las líneas uno y dos la línea uno el soterramiento del metro a su paso por urduliz que como ha podido comprobar también está en nuestro programa el

en la línea dos la puesta en servicio del tramo santurtzi kabiezes lógicamente esto también tiene un costo

y todo ello sin olvidarse tampoco de seguir trabajando en el desarrollo

del metro no quedan en programa electoral no quedan como dijo el día veintidós no quedan dormidas en algún cajón de las promesas electorales son proyectos de futuro inversiones a largo plazo como lo dijo la consejera debiera saber y además estoy seguro de que lo sabe que un proyecto de este tipo requiere estudios informativos declaraciones de impacto ambiental proyectos constructivos proyectos de instalaciones y servicios etcétera

se renuevan cada cuatro años hay elecciones y se renuevan en su caso

y la ciudadanía evalúa y valora lo realizado no voy a repetirle cómo están los estudios y trabajos técnicos porque la consejera hizo un sucinto

emateko pero parece que esto no sé si le interesa no debe vender electoralmente

usted señora llanos una inversión tan importante requiere compromiso seriedad y rigor y no se hace de la noche a la mañana como usted debiera saberlo y lo sabe además nos habla de retrasos

prevista su finalización para el dos mil diez y que ahora se habla de dos mil diecinueve

calma y sosiego hablaba también evidentemente que los vecinos de errekalde de matiko y de galdakao quieren que llegue el metro a sus barrios pero también hay que analizar las disponibilidades económicas y las prioridades eso

y eso es lo que se está haciendo tanto el gobierno vasco como la diputación foral de bizkaia

son garantizar los servicios sociales la sanidad la educación la protección social y la reactivación económica y esto también para los vecinos de errekalde de matiko y de galdakao y todo ello teniendo en cuenta el rigor presupuestario

diciendo que se habían pasado cuatro pueblos con la aplicación de medidas de austeridad rigor presupuestario que por tanto les debiera sonar a los representantes del grupo popular y que con iniciativas como estas parecen desconocer decía que aquí la situación económica es mejor que en otros lugares quizás también es gestión

con su inestimable apoyo se multiplicó por diez la deuda de este país rigor presupuestario el gobierno vasco ha cumplido con el control déficit público impuesto por su partido desde madrid y como decía la consejera es un gobierno responsable con el gasto

y al equilibrio territorial usted hablaba de las líneas cuatro y cinco del metro pero como le mencionaba antes también están la uno dos y tres el metro de donostialdea la ampliación del tranvía de gasteiz la eliminación de pasos a nivel y un largo etcétera que también están en nuestro programa electoral en nuestros compromisos decía que

no se harán nuevas inversiones en el metro de bilbao hasta finalizar las actuales obras de la línea tres como bien hemos dicho la línea tres finalizará a comienzos del próximo año pero sí que parece claro

no puede ni debe meterse en más proyectos de los que se puedan financiar o pagar el gobierno vasco como le dijo la consejera y este partido al que represento sigue manteniendo su apuesta originaria por el desarrollo de metro bilbao otros han subido

hemos llegado a una transaccional con el grupo socialista al que agradezco su predisposición a llegar a un acuerdo que no voy a leer la ha leído el señor elola y por tanto no voy a repetir

cronograma de la finalización de los estudios y proyectos técnicos que permita

oportunas tanto al gobierno como a diputación y nos parece prudente que es conocer el alcance total de las inversiones necesarias estamos hablando del orden de seiscientos millónes de euros para poder poner sobre la mesa una propuesta concreta y que sea el nuevo gobierno el que en coordinación

creemos que es más razonable y realizable que lo inicialmente planteado por el grupo popular y por ello solicitamos el apoyo al resto de los grupos de la cámara besterik gabe eskerrik asko

presidenta la señora llanos nos plantea que instemos al gobierno vasco a que antes de que finalice el actual periodo de sesiones es decir en apenas mes y medio presente los plazos de inicio y finalización de las líneas cuatro y cinco

como muestra del impulso necesario a estas líneas yo entiendo que es una moción que lo que trata seguramente es de presionar al gobierno de ponerle en evidencia de recordarle cuál es el programa electoral del partido nacionalista vasco de echarle en cara que determinados trabajos que tendrían que haberse realizado ya a estas alturas todavía no han sido llevados a cabo y por lo tanto utiliza esta moción para todo ello a nosotros nos parece que esta moción es imposible de llevarse a cabo y tampoco somos partidarios de instar

a cabo determinadas infraestructuras que siendo necesarias pues quizás no sean tan prioritarias como algunos grupos señalan que

muchas cosas hay que tener en cuenta la situación económica hay que tener en cuenta la situación presupuestaria hay que tener en cuenta las necesidades reales de miles de ciudadanos hay que tener en cuenta la evolución de la economía hay que tener en cuenta también el inmenso gasto superfluo que sigue existiendo en euskadi y en definitiva creo que hay que hacer una

sobre el uso de nuestro dinero público qué se hace con él a qué se destina y si efectivamente de ese modo se da respuesta a las necesidades reales

del metro de bilbao efectivamente las líneas cuatro y cinco son de esas infraestructuras necesarias que tienen que llevarse a cabo

a día de hoy cuánto de prioritarias son cuánto de urgentes de dónde quitamos para que estas infraestructuras puedan llevarse a cabo cuanto antes si es que efectivamente se pretende que se lleven a cabo

cuáles son nuestras prioridades esta expansión del metro cuanto de urgente es cuánto de prioritaria estas son las preguntas que nosotros querríamos hacer porque estamos hablando evidentemente hoy de un asunto muy importante

dinero público yo prefiero hablar del estado del bienestar de la sanidad de la educación del gasto social eso sí que creo que es

y aunque determinadas infraestructuras también son realmente importantes no somos partidarios de instar al gobierno a que acelere determinadas actuaciones cuando la situación económica es la que es y cuando tantos ciudadanos sufren en el día a día la escasez de recursos públicos

a sus necesidades vitales por otro lado el argumento fundamental de esta moción o de cualquier otra creo que tampoco puede ser el programa electoral del partido nacionalista vasco o las promesas del partido nacionalista vasco el asunto es cuánto de prioritario es este proyecto en concreto para cada uno de los grupos

en fin nos sentimos más cercanos a la transaccional firmada por el partido nacionalista y el partido socialista de euskadi porque además como decía al principio la moción del grupo popular parece poco realista más allá de que ponga en evidencia un incumplimiento del partido

sentimos más cercanos a la transaccional firmada por el partido nacionalista vasco y por el grupo socialista nos parece más realista se señala que esta infraestructura además es necesaria y tiene que llevarse a cabo ustedes se atacan unos a otros

no avancen incluida esta es posible que en este caso todos ustedes tengan razón porque además quizá la cuestión

que no puede cumplirse tanto en campaña electoral como en precampaña como

ese es el problema que hay en política que hay partidos políticos que hay gobiernos que prometen llevar a cabo determinadas actuaciones aun sabiendo que es prácticamente imposible que se lleven a cabo

se comprometen este sí que es un problema que tiene que recordarse y que debe censurarse pero en todo caso la clave es determinar los recursos de los que disponemos también del inmenso gasto superfluo en el que seguimos incurriendo y las necesidades de los ciudadanos sus prioridades y a partir de ahí dar respuesta en definitiva las líneas tres y cuatro del metro de bilbao son necesarias y consideramos que son un proyecto

con seriedad y con rigor nosotros no somos partidarios de instar al gobierno vasco en este asunto concreto a acelerar determinadas actuaciones cuando pensamos que los ciudadanos tienen otras necesidades seguramente más urgentes más allá de que este también sea un asunto importante
por el que merece la pena ocuparse por esto votaremos a favor de la transaccional gracias eskerrik asko maneiro jauna

bien brevemente para referirme a algunas afirmaciones de otros portavoces con relación a upyd aunque no está lo leerá después

en su sanidad pero también creemos que es apostar por los ciudadanos apostar por un transporte más eficaz por un transporte público que les permita esa movilidad y desde luego sí quiero dejar claro que para el partido popular del país vasco sí es una prioridad la línea cuatro y cinco y lo ha sido siempre y con respecto a acelerar actuaciones hombre pues teniendo en cuenta el tiempo que llevan estas líneas

diccionarios diferentes porque hablar de aceleración en la construcción del metro de bilbao y de las líneas del metro de bilbao con los retrasos que conlleva pues me parece

que se puede es verdad que se podría contar con los ciudadanos y que los ciudadanos diesen su opinión yo creo que los ciudadanos que los vecinos tanto de galdakao como de bilbao la han dado y sí

y en las elecciones a las juntas generales de bizkaia eh bildu concretamente en galdakao apostaba precisamente por establecer en sarratu

no sé si es que ahora se ha cambiado de opinión con relación al partido socialista hablaba

la cuestión está en la diferencia del tratamiento de las exigencias del partido nacionalista vasco cuando se trata de exigir a los demás

insistiré y no es cuestión de tomarles el pelo yo creo que además

de la otra institución que está implicada en este asunto que efectivamente es la diputación

las palabras que dijo fue la línea cinco tiene que esperar a la próxima legislatura a la próxima legislatura eso significa

a construir y con respecto que no se ha podido hablar de esto y que lo ha impedido el señor ruiz

con relación a este mismo punto en el que supongo que se reiterarán los mismos argumentos que hoy se están dando aquí y con relación al partido nacionalista vasco habla de compromiso

exigimos al gobierno un compromiso en firme y una fecha concreta a nosotros no nos vale con que se diga que se hará lo antes posible

se pedirá que se facilite una planificación presupuestaria y técnica para que ese compromiso se cumpla eso son peticiones que el partido nacionalista vasco hace al ministerio

que se ponga sobre un papel esos compromisos porque no le vale lo que se dice con una diferencia y es que el compromiso del gobierno de españa con relación a la y vasca en esta legislatura está más

más que probado por las dotaciones presupuestarias que han tenido en todos los ejercicios el compromiso de este gobierno con la línea cuatro y cinco

cero cero cero compromisos

a las disponibilidades presupuestarias dicen que igual es que ustedes tienen más dinero por su gestión hombre porque no han hecho nada porque no han hecho nada claro que tienen

en concreto en las líneas cuatro y cinco no han hecho nada en la línea tres un retraso

tenía que estar hace mucho tiempo y ahora va a estar en el dos mil diecisiete ustedes

para no quedarse fuera de la foto pero ni ustedes mismos estaban seguros de que ese dos mil dieciséis porque no estaban implicados económicamente con ello ya le digo ustedes exigen a los demás lo que y ustedes

de verdad claro calma y sosiego mire estas fotos estas fotos

la única manera que pueden ver el metro los vecinos de rekalde verdad y los vecinos de galdakao aquí en estas fotos

proyectado que se hablaba de los estudios informativos que se iban a finalizar al año siguiente

claro que es cuestión de disponibilidad presupuestaria y cuestión de a dónde se destinan

los recursos económicos y sí son una prioridad o no pero si hasta desde el propio metro y hablando de la línea tres se dijo que si se ponía más recursos económicos se aceleraba la construcción

en esto es igual si se dota presupuestariamente para la construcción y yo le digo por qué en etb este gobierno no tiene ninguna pega ninguna pega de comprometer casi quinientos millónes casi quinientos millónes de aquí a cuatro años y sin embargo tienen ustedes mucha pega en comprometer seiscientos millónes

porque para el partido nacionalista vasco etb sí es una prioridad y sin embargo ni los vecinos de bilbao ni los vecinos

no son para ustedes una prioridad y por eso no quieren compromiso porque si no

establecer los plazos de inicio y establecer un compromiso presupuestario era perfectamente posible
amaitzen joan es cuestión de voluntad y de compromiso que ustedes no lo tienen nada más muchas gracias eskerrik asko euskal sozialistak elola jauna bertatik

yo entiendo a la señora llanos en su intervención y la motivación que ha tenido para presentar esta moción yo entiendo su enfado yo entiendo que efectivamente tiene mucha razón en muchas de las cuestiones que ha planteado y sobre todo la razón por la cual ha presentado la moción

a la intervención que tuvo la otra vez a la interpelación es que es verdad muchas de las cosas es verdad nosotros también somos críticos con este gobierno vasco

en la puesta en marcha de las líneas cuatro y cinco ha sido el partido socialista

ha motivado a que se incorporen partidas presupuestarias no otros grupos nosotros por responsabilidad porque entendemos que es una cuestión de responsabilidad posibilitar los presupuestos los tres últimos en esas partidas en las cuales hemos negociado hemos metido partidas para las líneas cuatro y cinco para esos estudios para esos proyectos ahora lo que pedimos es

un cronograma para ver en qué situación están cuanto antes la próxima legislatura el futuro parlamento y el futuro gobierno ya tenga material

para poder ejecutar en el plazo más breve posible nosotros en cuanto a las intervenciones o las dudas o la reflexión que ha hecho

ha puesto de alguna manera una serie de claves sobre la mesa

la señora otegi también ha planteado el mismo tema las dudas en cuanto a prioridades

bueno decía que los dos apuestan sobre todo la intervención de la señora otamendi

hablaba de que benetakoak beharrak diren zalantzan jartzen zituen hombre es que azkenekoan

bai eskerrik asko presidente andrea nos dice la señora llanos que para el partido popular las líneas cuatro y cinco es una prioridad y lo ha sido siempre como decía bienvenidos

el metro no era una prioridad para ustedes habla de las declaraciones del diputado foral las

de bizkaia dijo que hasta finalizar la línea tres lo cual

en metro bilbao y lógicamente está supeditado a dos cosas

la realización de estas líneas a la evolución de la recaudación y a las prioridades como aquí ha quedado de manifiesto

en cuanto a la evolución de la recaudación y la disponibilidad presupuestaria antes la mencionaba algunos de sus compañeros de partido que decían en concreto

y la señora ana pastor también creo que la conoce en diciembre de dos mil trece decía adif licitará el nudo de bergara en el mismo momento en que tenga dinero suficiente por lo tanto el tener disponibilidad presupuestaria no es nada que se haya inventado ni este partido ni nadie por eso decía que

habla de las disponibilidades presupuestarias siguiendo hablando de las disponibilidades presupuestarias y que nosotros decíamos que es fruto de la situación más boyante que aquí tenemos es fruto de la gestión que se ha hecho en este país

le hablaba de lo que se ha hecho en transportes esta legislatura además del soterramiento de urduliz

y le voy a poner el ejemplo de que el setenta y cinco por ciento del presupuesto se dedica a político sociales cuatrocientos cincuenta millónes de euros

dígalo hay que priorizar y nosotros en esta legislatura y este partido tiene un compromiso con las personas y es su prioridad en este momento sin dejar de lado otros proyectos

yo pensaba y antes hablaba de oportunismo electoralista pues bueno yo creo que sí que esta moción

yo conociendo a la señora llanos he indagado y digo será que la señora llanos y el partido popular

la matraca durante toda la legislatura con la líneas cuatro y cinco con preguntas orales escritas interpelaciones

es que así yo no lo he encontrado únicamente he encontrado una pregunta que no es suya precisamente

donde se le contesta precisamente lo que aquí se está diciendo que se está haciendo un gran esfuerzo inversor por

y es más se le dice lo que se está haciendo en la línea cinco y en la línea cuatro y se dice

ha renunciado a la ejecución de los proyectos de las líneas cuatro y cinco del ferrocarril metropolitano de bilbao por tanto como puede ver hay un compromiso hay un compromiso de este partido que está en nuestro programa electoral y creemos que son proyectos necesarios pero también esa gestión que usted critica

exige actuar con responsabilidad seriedad y rigor

hemos llegado al acuerdo de que antes de finalizar la legislatura se presentará el cronograma de finalización de los trabajos y estudios técnicos para con posterioridad

evolución de la recaudación y previsión de la recaudación y prioridades de cada momento y para finalizar agradecer a upyd aunque no está el apoyo manifestado en la enmienda transaccional
entre nuestro grupo y el grupo socialista besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna

egiten da actualmente hay más de sesenta millónes de personas refugiadas en el mundo un tercio de las cuales son mujeres y niñas hay que decir que el ochenta por ciento de estas personas refugiadas están fuera de las fronteras europeas ante el mayor

la respuesta de la unión europea a la par que inmoral es ilegal y completamente criminal inicialmente habían establecido un reparto de personas refugiadas esas famosas cuotas queriendo vender la imagen de imagen de solidaridad

un miserable cero coma tres por ciento de su población cuando recordemos que desde dos mil quince más de uno millón de personas han intentado cruzar las fronteras europeas en busca de su legítima protección internacional países como líbano

el equivalente a un veinte por ciento de su población si europa equipararía este porcentaje tendría que acoger a ciento treinta y cinco millónes de personas y por

hasta el punto de llegar a firmar un contrato porque no es acuerdo señorías es un contrato de mercadeo con turquía sí esa turquía de erdogan que está exterminando al pueblo kurdo

que está vulnerando de manera sistemática los derechos del pueblo kurdo que bombardea a diario a la población kurda sí

y con luz verde para campar a sus anchas y seguir vulnerando los derechos del pueblo kurdo en este contrato establecido

le permiten a turquía retomar las negociaciones en materia de adhesión a la unión europea también

las ciudadanas turcas no tengan visado a cambio de como decía hacer la vista gorda en materia de derechos humanos este acuerdo del uno por uno firmado

devuelta a turquía desde europa se reubica a una persona refugiada siria solo siria dejando de lado a nacionalidades como iraquíes palestinas afganas etcétera siendo devueltas estas personas de manera automática a sus lugares de origen lugares que representan

otras vías alternativas de entrada a las fronteras europeas además

que están actualmente tiradas en las fronteras griegas que están en los campos oficiales campos improvisados o campos de detención como el campo de moria en el que

al menos pasando un vaso de comida por la valla podrán tener algo que llevarse a la boca en un solo día

un estado tan solo un estado miembro podría haber vetado este acuerdo podría haber vetado este acuerdo ilegal pero todos han aceptado la ilegalidad todos han aceptado cargarse de golpe y porrazo el convenio tan importante como es el convenio de ginebra

internacional a las personas refugiadas múltiples convenios internacionales en materia de derechos humanos y también los propios convenios establecidos por los países miembro de la unión europea

de estas políticas de la unión europea de invasión imperialista de expolio de recursos naturales de venta de armas

con sus hordas mercenarias frente a países indefensos y también

de malos tratos y de la negación de su legítimo derecho a la protección internacional incluso de la muerte como pudimos ver con el hombre quemado en idomeni o esta misma semana

turcas en los campos de refugiados si estos países que dilapidan millónes de euros para financiar a la otan quisieran una solución esa sería principalmente la de sacar

como no podía ser de otra manera evidentemente en este sistema patriarcal las mujeres y las niñas son las mayores víctimas de estos desplazamientos forzosos sufren todo tipo de agresiones sexuales explotación laboral y sexual todo tipo de acoso y vejaciones en su mayoría son familias que viajan de monomarental

con lo que el trayecto migratorio se convierte en un verdadero calvario para ellas

recogiendo cientos de testimonios en los que las mujeres relatan las múltiples violencias vividas en todo su trayecto migratorio por parte de las mafias por parte de las policías en la frontera o de otras compañeras

refugiados también en suelo europeo señorías también en suelo europeo las mujeres relataban como preferían dormir por ejemplo en playas como las de croacia antes de dormir en campos de refugiados

había algo que se repartía a diario y eran preservativos porque sabían que en sus múltiples violaciones iba a ver embarazos

para intentar que fueran los menores embarazos posibles recordemos además que un doce por ciento de las personas refugiadas son mujeres embarazadas que no cuentan con ningún tipo de garantía en ninguna de las fronteras sí también en las europeas ningún tipo de garantía para su integridad física y las de sus hijas e hijos la situación de los niños es exactamente igual más de diez mil niñas y niños refugiados desaparecidos desaparecidos tienen un destino absolutamente terrorífico trata con fines de explotación sexual tráfico de órganos explotación laboral infantil señorías toda esta realidad en suelo europeo todo ello en suelo me avergüenza a día de hoy y me repugna ser parte de esta unión europea es muy importante mencionar que todas estas vulneraciones de derechos humanos tendremos

de primera mano gracias a una propuesta hecha por euskal herria bildu que ha sido aceptada por esta cámara de viajar a los campos

estaremos allí para denunciar para seguir con esta denuncia sobre la masacre que también está favoreciendo la unión europea

también hay que decir que hemos firmado una enmienda transaccional con el partido nacionalista vasco y con el partido socialista que nos parece significativo en la medida en la que

acuerdo entre la unión europea y turquía defiende la universalidad del derecho

y también defiende la creación de un intergrupo parlamentario para velar por la garantía de los derechos de las personas migrantes y refugiadas independientemente de periodos legislativos también asimismo reconoce el papel clave y fundamental de la sociedad civil de la sociedad

que han demostrado estar por encima de las instituciones sí también por encima de esta institución que está enseñando la otra cara de europa esa europa solidaria abierta luchadora y combativa es importante destacar que

en cuanto a sus competencias en materia de sanidad educación y sobre todo servicios sociales para estas personas refugiadas pero también en materia en una materia que es fundamental y es en sensibilización de estas personas

que se plasmara de la forma que queríamos nos parece muy tímida la forma en la que se ha plasmado porque consideramos que el gobierno vasco tiene que estar a la altura de las circunstancias y tiene que tomar un papel proactivo en una situación

viviendo es fundamental la lucha de las organizaciones sociales pero también es fundamental la respuesta institucional y se espera que estén a la altura de las circunstancias

estamos hablando de que en otro escenario no estaríamos pidiendo

estaríamos nosotras y nosotros moviendo ficha estarían entre nosotras y nosotros muchísimas personas de muchos lugares diferentes conviviendo y enriqueciéndonos desde la diversidad una última reflexión esta unión europea hemos comprobado que es irreformable es completamente irreformable a esta unión europea criminal frente a esta unión europea del poder financiero frente a esta unión europea que sí que da

está esa ciudadanía europea europea que toma las calles desde el internacionalismo

o franceses en busca de esa europa demostrando que otra europa esa europa basada en los principios de ciudadanía global y solidaridad entre los pueblos es posible porque frente a esa europa farsista de fronteras cerradas y vallas acuchilladas

de corazón mente y brazos abiertos para convivir y sobre todo para recibir a todas aquellas personas

porque es fundamental recordar otra cuestión y es que solo el pueblo salva al pueblo ongi etorri errefuxiatuak eskerrik asko

una vez más debatimos en esta cámara sobre el mayor problema humanitario político y económico de la actualidad como es el flujo migratorio de millónes de personas desde lugares en conflicto en oriente próximo y áfrica hacia la unión europea

que pretendía dar solución humanitaria a los desplazados y refugiados por razones de conflicto es un problema mundial que afecta a unos sesenta millónes de personas que en el área que nos ocupa tiene una primera realidad en los países más cercanos a las zonas de conflicto como son jordania

irán o turquía y que tiene como segundo escenario europa como espacio

una patria que les reconozca como ciudadanos con sus derechos y deberes de esos millónes de personas que esperan en la puerta de europa muchos de ellos pagan cuantiosas sumas a los traficantes

el reto de la unión europea era el de crear vías seguras para el acceso a nuestro territorio y recibirles de acuerdo con los acuerdos internacionales en la materia pero sus gobiernos no han actuado con la altura moral que se esperaba unos como el grupo de visegrado formado por países del este propugnan la europa cerrada a cal y canto para los inmigrantes otros

quieren que haya un reparto equitativo de la carga y luego están los que miran

es el mejor ejemplo es evidente que los gobiernos de los estados de la unión europea

actuado según el imperativo moral kantiano que dice no hagamos a otros lo que no querríamos que nos hicieran a nosotros la unión europea debió afrontar el problema desde el punto de vista de las personas que sufren que necesitan acceder a los recursos sanitarios de educación y de otra índole social respetando su origen y creencias sin embargo

y pactar con el gobierno de turquía la creación de una especie de sala de espera permanente en su territorio a cambio por supuesto de importantes cantidades económicas

en moneda de cambio en la transacción el vergonzoso convenio se firmó con un país que no es precisamente seguro en materia de respeto de los derechos humanos de todos

operando una importante regresión en lo que a libertades públicas se refiere

o la creciente represión a los kurdos son buenas muestras de ello turquía se convierte

y por ese trabajo se le dan seis mil millónes de euros y se reanudan las negociaciones de adhesión a la unión europea pero es que además con la firma de ese convenio

que toda persona tiene para acceder a la condición de refugiado se abre la vía a las deportaciones colectivas y esto señorías es una violación flagrante del derecho

como organismo correspondiente de la onu y otras ong especializadas hayan denunciado el convenio y se hayan negado a colaborar esta actitud del consejo europeo

es en principio una muestra de la incapacidad para afrontar a tiempo y de forma adecuada la crisis de los refugiados provocada por los conflictos

pero además puede serla puntilla a la idea de una europa unida políticamente

firmados por veintiséis países europeos que debía aplicar la idea de libre circulación de personas entre ellos están absolutamente congelados los acuerdos de dublín de mil novecientos noventa

que pretendían asegurar idénticas condiciones de acceso de refugiados a todos los países de la unión se ven suspendidos ante la primera situación de grave emergencia

del peligro en que se encuentra europa como proyecto de futuro y de la crisis a la que se aboca el sistema internacional de asilo pagar a turquía para que actúe como filtro

y se convierta en un elemento disuasorio para quienes pretenden llegar a europa no va a acabar

la búsqueda de acceso se trasladará a otros puntos a otras costas de la ribera europea del mediterráneo ante esta situación el gobierno de mariano rajoy

evasiva remolona distante sin adquirir compromisos o sin cumplir los contraídos este gobierno del pp se comprometió a reasentar y reubicar hasta a

hace pocos días solo lo había hecho con dieciocho mientras millónes de personas huyen de la muerte y de la barbarie este gobierno solo es capaz de cumplir con una ínfima parte de su compromiso la sociedad española ha demostrado que es solidaria con el problema suscitado

para que puedan acogerse al número de personas comprometido muchas comunidades autónomas y ayuntamientos

no pierda el tiempo sin atender este asunto de extrema gravedad que actúe

como es su postura habitual el último ejemplo de esta actitud solidaria la dieron ayer mismo los nueve alcaldes socialistas de la comunidad autónoma vasca los alcaldes de irun

iruña de oca y moreda de álava han remitido una carta al presidente del gobierno en funciones mariano rajoy en la que le solicitan y cito textualmente

y autorice con carácter perentorio la llegada del número de refugiados que corresponde a cada municipio y que se les conceda el derecho fundamental

humanos nos obligamos a dar asimismo la comunicación exige que por tradición historia y sentido democrático

a tantas personas como seamos capaces de acoger estos alcaldes socialistas

recogiendo ropa y otros artículos de necesidad para enviar a los campos donde se hacinan los refugiados y manifiestan cómo ciudadanas y ciudadanos están dispuestos y ansiosos

nosotros esperamos que este ejemplo cunda y que sean muchos más los ayuntamientos vascos que se sumen a la iniciativa también pedimos al gobierno vasco que actúe en consecuencia y que además de ir preparando las infraestructuras y medios para la acogida de las personas refugiadas

con otras comunidades autónomas para reclamar al gobierno central que sea leal con los compromisos adquiridos y cambie su actitud pasiva por una activa

el gobierno vasco también debería dirigirse al gobierno en funciones para que este valorase la

la cuota que nos corresponde como ocurre en toda crisis humanitaria

existen situaciones límite que requieren actuaciones preferentes como son las familias con niños o con discapacitados

las madres solas con hijos las reunificaciones familiares estas situaciones deben ser objeto de medidas especiales de protección por parte de las instituciones como he expresado anteriormente yo creo firmemente que la mayoría de nuestra sociedad es solidaria con las personas refugiadas pero no es menos cierto que en europa para mucha gente como dijo bertolt brecht

son presagios de malas noticias y de ahí surge el miedo y el rechazo hacia quienes nos recuerdan la vulnerabilidad de nuestra posición y la fragilidad de nuestro bienestar

los socialistas pensamos que todas las instituciones democráticas debemos contribuir con los medios disponibles a paliar el sufrimiento pero también es nuestra responsabilidad actuar para que crezca la solidaridad que la explosión de sentimientos fraternales

en este sentido hemos propuesto y ha sido incluida en la enmienda transaccional que vamos a aprobar la constitución inmediata

desplazarse de sus países de origen identificar su estado y conocer sus necesidades en definitiva señorías queremos convertir en una preocupación permanente de este parlamento
lo que hay estamos manifestando aquí eskerrik asko eskerrik asko unzalu jauna

presidenta consejeros consejeras señorías algunos

sobre una unión europea fascista sobre una unión europea criminal yo no sé si

no compartimos entendemos absolutamente injustas esas afirmaciones

para nosotros europa sigue siendo un proyecto de futuro de democracia y de respeto a los derechos humanos y en ese sentido a pesar de

en ella y también tenemos que decir que estamos convencidos de que españa asumirá sus compromisos como ya lo ha hecho ya lo ha dicho y se ha comprometido

sí señora presidenta la situación de los refugiados no es un espectáculo edificante hay que hacer algo y rápido con más intensidad y mas acogimiento mejorar la capacidad de los países en lo relativo a la acogida mejorar que europa articule esa política superar además

insolidaridad españa no es uno de ellos

y a que se articulasen políticas y pasos en el seno de la unión con garantías y entre todos y es complicado y difícil negociar en el seno de la unión políticas que den

unir las voluntades de veintiocho estados miembros de la unión europea en una crisis como esta

con gobiernos de partidos socialistas entre ellos y se hacen esfuerzos

de marzo esa declaración que decía que europa

de miles de personas que huyen del terror la guerra en sus países de origen y que buscan un espacio de protección seguridad libertad a los derechos humanos se decía que esa crisis

la política de asilo inmigración debe ser una política común en el marco de la unión europea eso es importante que lo entendamos todos

eso es complicado y difícil pero hay que articularlo es esencial la colaboración de los países de tránsito de origen y la coordinación con estados miembros y españa debe de continuar

de la unión para definir unos procedimientos acordes con la situación y el incremento de fondos destinados a ese fin

y el cumplimiento de la legalidad como base para la efectividad de todos los derechos

esta postura que encontró ese respaldo unánime recientemente también encontró un respaldo unánime en el congreso de los diputados en la legislatura anterior cuando

común de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en torno a la crisis de los refugiados eso es difícil efectivamente de acuerdo cómo se trabaja conjuntamente el superar los problemas y hacerlo con una posición firme en este caso de españa nosotros entendemos que el gobierno lo está respetando y el pasado siete de marzo de dos mil dieciséis los jefes de estado y de gobierno de la unión europea aprobaron una declaración en la que acordaron trabajar

a partir de ahí el propio congreso de los diputados por total mayoría hizo una serie de cuestiones y de manifestaciones que han sido seguidas y que han sido respetadas por el gobierno de españa en su negociación se manifestó la oposición a la

con turquía que establezca expresa o indirectamente la posibilidad de proceder a expulsiones colectivas

imprescindible que la declaración o acuerdo garantice de manera expresa que cualquier expulsión a turquía solo sea posible cuando la misma sea adoptada tras la conclusión definitiva del correspondiente expediente de asilo con todas las garantías que los acuerdos

alcancen con turquía contengan garantías del cumplimiento de la legalidad internacional y del respeto de los derechos humanos incluido los requisitos de la legislación europea de asilo es decir cuestiones concretas también

dicha legislación exige que exista la certeza de que se respete el principio de no devolución las personas puedan solicitar el estatuto de refugiado

interno también se exigió reforzar los mecanismos de control sobre el efectivo destino de la ayuda económica en favor de los refugiados

a acoger por la unión europea en función de la evolución de la crisis en los últimos meses

no gubernamentales internacionales y en línea con lo que muchos países están dispuestos a hacer ya sabemos que algunos países no están dispuestos a hacer un esfuerzo de acogida pero algunos como españa sí

establecerse los procedimientos pero españa ya lo ha dicho y su gobierno ha dicho está dispuesto a ser país de acogida efectiva de las cantidades de las personas del número de personas de lo que se considere en el seno de la negociación en la unión europea

promover el establecimiento de vías adicionales seguras de llegada y de reasentamiento de los refugiados visados humanitarios reagrupamiento familiar

trabajarlo y hay que hacerlo y hay que acordarlo veintiocho países hay que seguir trabajando hay que tener fe en ese acuerdo promover

especialmente los menores sin familiares que se encarguen de ellos o mujeres víctimas de violencia sexual o de género es decir esas cuestiones han sido planteadas

gobierno de españa en funciones en relación con estas cuestiones se podrán hacer las cosas mejor no cabe duda pero hay que acordar una posición en ese sentido para despejarla en el futuro

algunos consideran que las políticas europeas son equivocadas nosotros no nosotros consideramos que son

son acordadas no están siendo acordadas serán mejorables y habrá que hacer muchos más esfuerzos y efectivamente está el lastre de algunos países

pero el acuerdo y el hecho de ver las cuestiones con proporcionalidad y con esas características es el camino a transitar en esta grave crisis que tenemos

a intentar esforzarnos por arreglar los problemas que tenemos y no generar más problemas yo creo que ese el elemento fundamental

enmienda de transacción suscrita por los grupos parlamentarios nosotros estamos básicamente de acuerdo pediríamos que los grupos tuviesen a bien

dejarnos votar separadamente el punto dos en relación con la denuncia

dijo que ese acuerdo pues bueno estaba ahí que podía ser un parche pero que

ese acuerdo pero sí estamos en disposición de aprobar el resto de puntos que vienen en la enmienda de transacción así que si son tan amables

estamos de acuerdo con muchas de las cosas que se han planteado por los diferentes grupos también por los grupos que han firmado esta transaccional y estamos de acuerdo con todos y cada uno de los puntos de la transaccional creo que ha quedado una transaccional

muy clara muy incisiva que dice cosas a tener en cuenta cosas muy relevantes cosas muy importantes cosas que afectan a miles de personas a miles de seres humanos una transaccional que habla de la necesidad de respetar la legalidad vigente y evidentemente los derechos humanos de millónes de personas que tienen que ser bien tratadas y que tienen que ser atendidas

gran proyecto político que sigue siendo europa más allá de que ciertamente durante los últimos tiempos crece el pesimismo en relación a determinadas

tomándose desde europa creo que en fin en el futuro esto

y europa en fin volverá a ser ese gran proyecto que todos defendemos evidentemente estamos por lo tanto de acuerdo con cada uno de los puntos el primero propone que este parlamento

y de vulneraciones de derechos humanos por lo que exige a la unión europea y a sus estados miembros una respuesta humanitaria urgente basada en el derecho internacional de asilo los convenios internacionales y la carta de derechos

de la unión europea quizás sea el punto más importante el punto que resume todo el punto que viene a decir que estamos hablando de seres humanos que estamos hablando de personas como nosotros que estamos hablando de personas que tienen que ser bien atendidos y que además tiene que respetarse

lo fundamental creo que es el primer punto lo que primero se señala estamos hablando de personas estamos hablando de ciudadanos no pero sí seres humanos pudieran ser cuanto antes efectivamente ciudadanos de pleno derecho pero estamos hablando de personas que merecen todo el respeto y nuestra máxima atención y cuidado y también estamos de acuerdo con los demás puntos que se señalan mostramos también nosotros nuestro más absoluto rechazo y denuncia

de la unión europea con turquía que efectivamente vulnera múltiples normativas internacionales en materia

defendemos también una política internacional y de inmigración común manifestamos nuestro absoluto rechazo a las detenciones en campos de refugiados y al cierre de fronteras por parte

todos los esfuerzos para encontrar a los miles de niños refugiados desaparecidos exigimos al gobierno de españa a la mayor brevedad su compromiso de acogida

al gobierno vasco a colaborar con todas las instituciones implicadas para que las personas refugiadas puedan llegar a euskadi y disponer del acceso a todos los servicios y a los recursos públicos de los que también nosotros disponemos reconocemos evidentemente la extraordinaria labor desarrolladas

y la sociedad civil y nos comprometemos a conformar aquí un intergrupo parlamentario en defensa de los derechos de las personas

y refugiadas nosotros llevamos varios meses creo hablando claro en relación a esta cuestión el pasado día ocho de septiembre ya

que españa debe acoger como mínimo a los refugiados que establezca la unión europea y recordábamos que vienen para quedarse decíamos que españa debe cumplir las resoluciones de la unión europea como mínimo se trata de actuar para terminar con una situación insostenible

y protección de los derechos humanos decíamos también ya en septiembre del año pasado que los españoles tienen tenemos que saber que los refugiados políticos vienen para quedarse y van a tener en españa deberían tener en españa todos los derechos a excepción del voto tenemos que ser capaces de convertirles en ciudadanos

a malvivir o que vienen a guetos ya en septiembre también del año pasado nos sumábamos a las manifestaciones en apoyo de los refugiados convocadas por los sindicatos para aquel fin de semana y decíamos que el presidente del gobierno

de en aquel momento otros mandatarios europeos y señalábamos que la solución requiere una gestión en origen también y una verdadera unidad

ni siquiera la negociación debería ser absolutamente obligatorio estamos hablando de cuestiones que afectan a derechos y señalábamos también ya en septiembre del año dos mil quince que hay que superar el nacionalismo de los estados nación que

a la unión europea y ese gran proyecto político que queremos poner en marcha tenemos el problema de los nacionalismos pequeños que tratan de romper los estados de la unión europea y tenemos también el problema del nacionalismo de los estados nacionales que impiden la construcción europea en enero de este año

abominación y una barbaridad el bloqueo que está imponiendo el consejo europeo las medidas propuestas por el parlamento europeo y la comisión europea

huyendo de la guerra en oriente próximo nosotros ya hemos estado en los campos de refugiados nuestra eurodiputada pagazaurtundua denunciaba que

se ha convertido en los juegos del hambre decíamos que era una absoluta atrocidad lo que allí

y lo que se estaba cometiendo con los refugiados e inmigrantes

que se está cometiendo con los refugiados inmigrantes que están siendo retenidos en las islas griegas a la espera de su expulsión hacia turquía y comparamos su situación

de los juegos del hambre si alguien para pedir un derecho objetivo un derecho reconocido por el derecho internacional humanitario tiene que jugarse la vida es que todo

corrupto todo esto hemos venido diciendo durante los últimos meses dijimos que la situación era y sigue siendo absolutamente vergonzosa en fin creo que hemos sido por lo tanto meridianamente claros en relación a esta cuestión

de totalidad en la que algunos puntos se han incluido en esta transaccional y otros no en esta enmienda de totalidad defendíamos una política internacional y de inmigración común defendíamos y defendemos más integración europea el respeto escrupuloso

todo esto se ha incluido pero también proponíamos en esta transaccional

de los estados nacionales que como decía antes me parece algo

fundamental defendemos lo mismo en europa que en españa es mejor unir que separar es mejor derribar fronteras que levantarlas el nacionalismo pequeño o el nacionalismo grande igualmente nos perjudica a todos nosotros pero esto en concreto no se ha querido incluir en esa transaccional y también hacíamos mención al pacto

como modo también de defender a los refugiados que huyen de sus países de origen y proponíamos incrementar los medios presupuestarios materiales y humanos

dotar mejor a nuestros policías mejorar la integración y colaboración de las policías de los estados miembro perfeccionar la inteligencia y cortar

es importante para atender mejor a los refugiados y para poder actuar en origen no basta con atenderlos como merecen sino que de una forma o de otra hay que actuar en origen y ahí evidentemente hay muchísimas cosas por hacer

legal hay que cumplir el derecho internacional una solución humanitaria digna global e integral es decir no parcelada no pueden los ayuntamientos o no basta con que los ayuntamientos tomen determinadas decisiones de manera parcelada simbólicamente está muy bien y nosotros

común integral global por parte de la unión europea y evidentemente hay muchísimas cosas por hacer queda todo por hacer pero en todo caso como no podía ser de otra manera compartimos los puntos recogidos en esa transaccional y votaremos a favor de ella

ya lo dijo el gobierno hace un par de meses esta no es una crisis de refugiados sino la injusticia y la vergüenza del trato que sufren las personas refugiadas

esta injusticia este trato es el ejemplo de la crisis de valores que está sufriendo hoy en día la unión europea que antepone como les decía antes los valores instrumentales a la persona

y más que la comisión son sobre todo el egoísmo y el materialismo

los auténticos culpables de esta vergüenza y del tratamiento que se está dando a las personas refugiadas creo además que la última propuesta en la comisión europea de multar a los estados que no admitan y amparen

demuestra esta diferencia de actitud entre una institución y los estados miembros

este partido y el pueblo vasco en general ha expresado su compromiso europeísta por lo tanto ante

y la desaparición de los valores iniciales que constituyeron los fundamentos de la unión

y clamar la indignación el profundo disgusto y nuestra rabia ante lo que está ocurriendo todos los días en las fronteras de europa

han conocido éxodos masivos provocados por guerras por dictaduras

sin papeles hemos sido perseguidos y hemos sido refugiados

y por lo tanto debemos de dar cuanto antes una respuesta eficaz a la crisis de estas personas refugiadas y no simplemente como devolución

que también sino porque es nuestra forma de concebir la vida con la persona humana en el centro de nuestro proyecto y la respuesta que europa vaya a dar

de nuestro proyecto común basado precisamente en estos valores humanos pero de momento desgraciadamente no parece que la solución

simbolice el proyecto de una europa fundada en estos principios

es una renuncia a los valores y a los compromisos de la unión europea es la vergüenza de los jefes de estado

en un proyecto europeo común y al igual que el gobierno vasco reclamamos a la unión europea que aplique con claridad el triple compromiso de solidaridad responsabilidad y legalidad solidaridad que supone el deber humano de prestar auxilio con urgencia y sin dilación a quien se encuentra en situación de extrema necesidad y emergencia huyendo de las guerras responsabilidad que significa que europa

legalidad que obliga a que europa cumpla con el derecho internacional con la convención de ginebra con la declaración de los derechos humanos y con su propia carta

ni a este debate ni el anterior para hacer cosas para preparar la acogida de refugiados

pero por lo tanto nosotros instamos a la unión europea y a los estados miembros que cumplan con su promesa de acoger a los refugiados

inmediatamente desde el respeto a las personas y al derecho

de estos refugiados pedimos cómo no que europol redoble los esfuerzos para dilucidar

que según sus previsiones han desaparecido en europa

recordar aquí que hemos hecho un trabajo en común entre diferentes grupos

y que quiero agradecer también al señor maneiro por su apoyo a esta enmienda transaccional

dificultad para que el pp pida el voto punto por punto eskerrik asko

barrio que no comparten esa relación

nos hubiesemos asustado si ustedes la compartiesen pero es que no hace falta que mencionen esta cuestión cuando ustedes

en ceuta y en melilla sí gracias al gobierno del partido popular en el estado español

también este parlamento ha podido oír ha podido ser testiga y partícipe

en primera persona de esta trata de personas que se da en melilla de ver cómo lo mismo que turquía ahora está haciendo para la unión europea cómo marruecos

de carceleros cómo les evita que se manchen las manos de sangre algo que tampoco

que suceda con las quince personas asesinadas en la playa de tarajal quince personas asesinadas en un juicio que ha sido sobreseído simplemente porque el gobierno español ha legalizado lo que era ilegal las devoluciones en caliente con esa famosa ley mordaza que ha permitido que ahora sí lo que piden para otros con la boca cerrada no lo cumplan en las fronteras del estado español

sufran todo tipo de trata y vulneraciones de derechos humanos y esto está recogido en un informe por si tienen dudas y quieren leerlo

donde se constata esto que hoy aquí yo estoy diciendo

huyen de las guerras de la miseria de los conflictos existentes que son potenciales solicitantes de asilo se les niega esa petición

el gobierno español ha aprobado una ley ad hoc una normativa ad hoc en la que dicen que quienes soliciten asilo en las ciudades

no pueden circular libremente por el resto de la península por tanto evidentemente prefieren esperar a ser trasladas estas personas a algún lugar del península traslado que por cierto se da a los cie a esos

hay una campaña muy importante por parte de las organizaciones para el cierre de estos centros de internamiento para extranjeros que son verdaderos campos de concentración

desde ceuta o desde melilla con una orden de expulsión que automáticamente los migratiza los convierte en personas inmigrantes poniéndoselo muy complicada a las organizaciones sociales para que les puedan ayudar solicitando

hablaba de las bondades del gobierno español en materia de asilo le vuelvo a recordar que un solo estado miembro uno solo podría haber vetado este acuerdo infame al que ha llegado la unión europea y turquía y

de la vergüenza y el ridículo que hace el estado español en el que le devuelve una resolución

aceptando que esta persona ha sido torturada aceptando que si vuelve a marruecos corre peligro su vida pero sin embargo le deniega

esta es la realidad mientras en un país como alemania ha habido

personas solicitantes de asilo a las que le han aprobado el asilo

muchísimo tiempo porque hay personas que llevan esperando no un mes ni dos ni un año hasta dos y tres años llevan esperando el asilo en el limbo jurídico sin ningún tipo de protección

autonómicos en la medida de su voluntad política esa es la realidad que se vive aquí no tenemos que irnos a las fronteras de grecia

donde lo que se está cometiendo verdaderamente son vulneraciones sistemáticas de derechos humanos con la responsabilidad directa del gobierno del estado español del partido popular es efectivamente lo que no queremos

esperemos que en estas elecciones y hablando en términos también migratorios se desplace se abandone

la formación del partido popular que está permitiendo esta vulneración de derechos humanos y que ha firmado este acuerdo criminal eskerrik asko urrea

la exhibición de símbolos de cualquier índole o de contenido en la tribuna es para saber y preparar nosotros también porque en cualquier caso lo que supone es desvirtuar el debate e introducir elementos que poco

gracias presidenta bien algún portavoz de los que ha hablado de falta de altura de miras en relación con la posición del gobierno de españa

altura de miras en toda esta negociación ha sido el español

y de crear una opinión conjunta en el seno del congreso de los diputados hacer bandera de ella en sus negociaciones en bruselas yo creo que eso hay que valorarlo así otros países con gobiernos socialistas no lo han hecho pero

y en ese sentido yo creo que eso es importante es la segunda ocasión que en el tema de los refugiados

logra tener una posición unánime y conjunta en el seno del congreso de los diputados y luego ir con ella a las negociaciones de la unión europea

son negociaciones de eso estamos hablando y hay que ir a negociar

que puedan ser pero son caminos o sea lo importante y además seguir construyendo seguir reuniéndose y seguir hablando y efectivamente poner de manifiesto las insuficiencias las deficiencias las dudas y seguir mejorando es una crisis humanitaria sin precedentes ustedes lo han dicho lo han reconocido desde la segunda guerra mundial y hay que unirse para superarla y para que la unión europea salga fortalecida

problemas en las posición de los estados no tanto

insolidarias y cerradas no es la posición del gobierno de españa y eso es lo que tenemos que tratar de construir es complicado vuelvo a decir pero

transcurrir por ese camino del acuerdo de la unión de activar elementos internos de cohesión como ha pasado en el congreso de los diputados que yo ponía en valor antes e ir así desde luego a europa y sí a veces dejando como vulgarmente se dice pelos en la gatera pero hay que tratar de buscar esa los principales países españa es de los principales que quiere la acogida que quiere tener políticas proactivas que quiere tener una actitud de acogida de asilo

de acordar y yo lo recordaba en la declaración conjunta y eso recientemente además el presidente del gobierno en el congreso de los diputados hizo mención a ello a su posición

la cuestión fundamental ya sé que es fácil decir en este momento

por insuficiente por mejorable manifiestamente porque hay que seguir avanzando en ella

la posición de la unión europea bueno criticarla o algunos ya

criticar también la actitud del gobierno de españa alguno de ustedes decían que miraba para otro lado alguno que no tiene altura de miras

en cualquier caso ese es el camino la negociación el acuerdo todavía somos un grupo y lo seremos y esa es la fe que tenemos de veintiocho países que con sus diferencias tiene que avanzar por ese camino de defensa de la democracia defensa de los derechos humanos y de respeto del derecho de asilo desde luego por ahí se tiene que seguir avanzando no sé si en este momento efectivamente la cuestión será

pero el asunto es que hay que seguir avanzando por donde se está avanzando por el acuerdo por la necesidad de unirse de hablar de esos temas y de seguir por ahí la señora urrea pues efectivamente ha empleado su tiempo en la descalificación

los temas en relación con el partido popular y señora urrea como yo decía anteriormente en la unión europea no es una cuestión de vetar usted le da importancia a que alguno de los países estableciese un veto y entonces qué construimos en relación a esta cuestión

fortalecerán una posición común y en la medida que lo vayamos negociando y que algunos países se convenzan de que hay que seguir dando más pasos no es una cuestión de vetos es una cuestión de camino es una cuestión de negociación ese es nuestro planteamiento

es nuestra posición y en este sentido y en esta posición saludamos y valoramos la posición complicada del gobierno de mariano rajoy en relación con esta cuestión con ir con ser capaz de crear en el parlamento español una posición conjunta

la posición preeminente en relación con el acuerdo con turquía eso

no lo reconocen vuelvo a decir estamos de acuerdo con la enmienda de transacción básicamente salvo con el segundo punto porque descalifica de una manera absolutamente radical

entendemos que siendo mejorable tiene recorrido muchas gracias eskerrik asko barrio jauna maneiro jaunak ez du hitzik hartu behar aguirre jaunak bai

aipatu du momentu batean la retirada de las tropas de todas las tropas eta ni ados nago honekin

de todas las tropas de todas las potencias hor

eta egia da y me alegra porque nosotros lo señalamos creo que

del mes de octubre y usted nos dijo que nos estamos escudando no detrás

para no intervenir no hay que hacer las dos cosas hay que intervenir con la unión europea

esas mafias esas redes de tratas de personas de mujeres

es impresionante señor barrio

usted pedía fe a los refugiados parece muy bien fe y paciencia pero cuando se está muriendo la gente

hay que actuar ya y el gobierno español se ha comprometido y tiene que cumplir con ese compromiso de la misma forma que el resto de los estados miembros el gobierno vasco está dispuesto a intervenir ya tiene un plan de acción que está en marcha las diputaciones también los ayuntamientos también están esperando recibir a esta gente eta bukatzeko

bai gracias con su permiso presidenta se está convirtiendo en práctica habitual el impedir

que cuando las enmiendas de transacción vienen además numeradas es decir puede haber una votación normal es

señora presidenta votaremos a favor de todo el texto

sailburuak legebiltzarrok bueno una aclaración soy marino

también que no hay ningún valor más importante para un estudiante que el obtener una gran formación cuando elige una carrera en la universidad y facilitarle esa gran formación es una obligación para la sociedad y para la ciudadanía crítica que con sus impuestos hace posible en nuestro caso que dispongamos de la universidad del país vasco euskal

hacer una buena universidad centro de conocimiento es también una obligación que en este caso

una obligación a la que especialmente deben responder los responsables que gobiernan la universidad pública que nos hemos dado haciendo de nuestra universidad una universidad abierta para los jóvenes y para el profesorado abierta internacionalizándola cómo no en todo caso también estaremos de acuerdo que es necesario que la universidad evalúe constantemente las necesidades de las carreras que se imparten en las mismas para responder adecuadamente a fenómenos que han venido a quedarse y que debemos afrontar como la globalización

en definitiva estaremos de acuerdo también en la necesidad de que nuestra universidad sea una universidad eficiente

sea responsable con los estudios que se impartan para que siendo eficiente se acerque a un mejor conocimiento con su objetivo de acercar a los alumnos y alumnas a la aplicación de sus conocimientos en el mundo real en un trabajo para que esa parte de nuestra universidad

a todo el sistema para que alumnos de otras nacionalidades puedan seguir sus estudios en euskadi para que en este caso hagamos posible que los que en su día fueron lo mejor de nuestra historia nuestros marinos los marinos vascos

les haga mejores la escuela superior de náutica y máquinas navales de portugalete

y el máster universitario en ingeniería náutica y transporte marítimo pero el alto nivel de formación de esta escuela no puede quedarse solo en la impartición de estas materias

en el que los futuros profesionales deberán desarrollar su actividad que de manera inexorable será la lengua inglesa repito una idea inicial es

al mundo profesional de los alumnos que eligen sus estudios las salidas ligadas al mundo profesional de los alumnos nuestros chicos y chicas de náutica tienen en el inglés su eje central el idioma inglés

lengua franca en todas las variadas actividades del comercio y transporte marítimo

de la lucha contra la contaminación marina particularmente la que se produce desde los buques

del control de tráfico marítimo de la actividad portuaria el practicaje del diseño de la construcción de buques de su equipamiento de la industria auxiliar marítima

de la clasificación de los buques y de otros muchos elementos que hacen posible el transporte por mar de mercancía y sus servicios hay multitud de razones históricas institucionales y tradicionales

tan destacado las instituciones inglesas han tenido a su cargo desde siglos atrás

y los problemas que surgen en su puesta de operación y han producido abundante legislación que en muchos casos se han estructurado en docenas de convenios

no se puede concebir hoy en día la navegación

así se ha reconocido desde siempre y así lo obliga el convenio internacional sobre normas de formación certificación y guardia

en españa al boe del siete de noviembre del ochenta y cuatro conocido por las siglas inglesas

dependiente de este convenio está el código de formación de carácter obligatorio en su mayor parte con recomendaciones para la mayor implantación de lo dispuesto

hasta los niveles detallados en el citado código en otras palabras nadie puede obtener ningún título de oficial de este puente ni de capitán así como de oficiales de máquinas

sin haber superado los niveles de conocimiento de inglés especificado es decir el conocimiento del idioma inglés no puede tener un carácter opcional

sino que tiene que ser obligatorio cuestión que no debe necesitar mucha justificación recuérdese

la universidad imparte enseñanzas y expide títulos académicos tiene

pero nadie puede embarcar y ejercer con un título académico los títulos académicos no son suficientes para ejercer a bordo pues carecen de contenidos esenciales y propios del ejercicio en los buques para ejercer a bordo son necesarios

los alumnos que están en posesión de los títulos académicos los canjean mediante un procedimiento por los títulos profesionales expedidos por la dirección general

a los alumnos que hayan obtenido su título académico sin el estudio del idioma inglés como decíamos antes es decir que un alumno que desee ser capitán u oficial de la marina mercante

sin superar los contenidos de inglés nunca recibirá no debería su título profesional

los años de estudio estas consideraciones se amplían mucho

profesional a bordo una vez que se sale del ámbito local todo sucede en inglés la radio el teléfono el ordenador

la seguridad los casos de salvamento las reparaciones los asuntos judiciales tan importantes hoy en día lo que se imaginen

hasta en nuestros congeladores atuneros congeladores es decir todo todo sucede en inglés y el interlocutor

y no tan importantes pero todo en inglés es decir los profesionales de la mar deben saber hablar y entenderse en inglés

entenderán que lo mismo debe aplicarse al escribirlo pero creo que no hace falta detallar y justificar entre otras razones para no alargar estos comentarios está reconocido y no hay nadie que lo discuta que el nivel de inglés que se alcanza superando los niveles establecidos

no son suficientes para adoptar a los alumnos de los exigentes compromisos que tienen en su vida real en inglés es decir considerar al idioma como una asignatura más

tantos créditos da conocimiento de inglés sin duda pero a bordo en la vida real se exige mucho más así se ha reconocido en las enseñanzas náuticas

que allí sí los alumnos acceden a la universidad sabiendo inglés habiendo tenido en sus estudios básicos inglés a estos estos países obligan en los dos últimos cursos al menos

se implantan se impartan en inglés sería un notable avance impartir tal como reclamamos por medio de esta proposición no de ley que todas las asignaturas de los cursos de formación marítima para capitanes jefes de máquinas y oficiales de ambos departamentos maquinas y puente

y demás material en lengua inglesa otro capítulo sería el refuerzo y por lo tanto la formación en inglés de los profesores que lo necesiten

el mundo profesional de los marinos está directamente ligado a la lengua inglesa tanto en los barcos como en las empresas navieras consignatarias astilleros

una escuela de referencia internacional en europa y una referencia clara para que los alumnos que estudien en la misma sean referentes en el mundo laboral marítimo los alumnos vascos que se matriculan en náutica

desarrollado ya sus conocimientos en los dos idiomas y el inglés les garantiza su salida profesional haciendo que nuevamente seamos referentes mundiales como lo éramos en su día que la carrera de náutica en sus grados y másteres se imparta en inglés va a hacer que los alumnos puedan acceder

haciendo así también normal que los alumnos de náutica de otros países puedan realizar lo que hoy no se da y es que su programa

les haga conocer y enriquecer portugalete bizkaia la margen izquierda

por ello deberían de aprobar esta iniciativa no me voy a referir al acuerdo que hemos visto más que en mi segunda intervención porque quiero escucharles porque es innegable que no se puede decir no a lo que proponemos

es ir en ese tratamiento que debemos hacer y es pertsonak helburu o ideologia helburu y nuestras personas las personas que van a estudiar náutica requieren de verdad

el grupo popular comparte la iniciativa presentada por los socialistas el sentido de su iniciativa y porque la consideramos además valiente

es necesario hablar aquí de lo que está pasando de los retos que tenemos en el futuro y de lo importante que es que adoptemos hoy medidas poder afrontar esos retos en los próximos años nosotros también desde luego queremos una universidad abierta y estamos convencidos

adoptar medidas como las que hoy por ejemplo se propone de manera concreta para la escuela técnica superior de náutica

el modo y la velocidad con que queremos afrontar desde nuestro sistema educativo y también desde la universidad la apuesta por el inglés el reto del inglés en los próximos años desde luego

nos acaba de explicar de manera detallada el inglés será la lengua de trabajo en la que los futuros

de la náutica desarrollarán su actividad esa va a ser su realidad la realidad a la que se van a tener

la lengua franca de la navegación y del transporte marítimo el inglés como asignatura desde luego nos parece

tenemos que ir mucho más allá y tenemos una oportunidad tenemos un gran reto pero creo que supone también una oportunidad para esa escuela superior

en la intervención del grupo proponente la oportunidad de convertir esa escuela

superior de técnicas náuticas y marítimas de que sea una referencia internacional pero claro para que eso se pueda dar exige tomar medidas hoy no podemos hablar de

impartidos completamente en inglés en el curso veintidós veintitrés si hoy ya no adoptamos medidas porque claramente eso limitará la posibilidad

para poder cursar esos estudios a miles y miles de

queremos que no tengan esa limitación y para eso nosotros estamos reclamando medidas desde ya creo que tenemos años por delante y que siendo ambiciosa la iniciativa es una iniciativa que nos pone frente al espejo de lo que el sistema educativo

exigiría desde luego una apuesta clara por el trilingüismo para evitar efectivamente que se limite el acceso

que fuera del sistema educativo no van a tener las opciones que quienes por su capacidad de renta sus familias les va a posibilitar aprender el inglés fuera de la escuela

condenar a quienes no tienen capacidad para estudiar y aprender inglés fuera de la escuela limitar sus opciones de futuro yo creo que la necesidad de que efectivamente la

de tener centros de referencia en inglés

en que cualquier medida en esta dirección limita el acceso pero claro no nos damos

por medidas como la que hoy plantea el grupo socialista lo que está limitando son las opciones las salidas profesionales de todos aquellos que decidan cursar esos estudios vamos a limitar absolutamente sus opciones

yo creo que la transacción deja claro que pnv y bildu son refractarios al inglés el nacionalismo está demostrando en los últimos años que es

no soportan hablar de apuestas de futuro en el sistema educativo que tenga que ver con las cuestiones lingüísticas y con las apuestas que está haciendo hoy todo nuestro entorno

de lo que hoy se firma nos vamos a quedar atrás porque esto ya es exponencial es decir llevamos hablando de esto diez años pero es que los próximos cinco se va a avanzar

va a avanzar muchísimo más nos vamos a quedar dormidos mientras el nacionalismo refractario al inglés nos va a colocar a la cola

educativo y que en los próximos años van a acceder a una universidad

del futuro sin el inglés no servirán para nada serán papel mojado no servirán para nada sinceramente creemos que habrá que exigir también responsabilidades a aquellos que teniendo la oportunidad de adoptar las medidas a tiempo

marinero pero tengo ascendencia marinera y además mi abuelo paterno murió en la mar quizá

voy a votar a favor de la iniciativa original más allá de que en nuestra enmienda de totalidad hayamos intentado digamos un poco extender la temática también

esta enmienda de totalidad que ha presentado upyd quizás tendría que haber sido de adición porque no es contradictoria en absoluto con lo que el grupo socialista nos ha propuesto casi un seis por ciento de los créditos impartidos en los grados de la upv según datos de dos mil trece son impartidos en inglés es decir los alumnos y

más de doscientos asignaturas en inglés y el casi catorce por ciento de los profesores están acreditados para dar asignaturas

extranjero como en otros ámbitos educativos partimos ciertamente de una cierta ventaja en comparación con el resto de comunidades autónomas sin embargo es necesario seguir avanzando en la implantación del inglés como lengua vehicular en aquellas materias educativas donde el inglés es el idioma principal o prioritario la globalización especialmente la globalización económica y tecnológica ha situado al inglés como el idioma

actividades la ampliación de las actividades comerciales ha hecho imprescindible el conocimiento de varios idiomas siendo el inglés el idioma preferente que se ha impuesto claramente

en el que sin duda alguna el inglés es también el idioma rey y es el desarrollo de internet que se ha consolidado como herramienta de negocio de comunicación

esto no hace más que reforzar la necesidad de conocimiento y dominio de este idioma que también lidera el ámbito tecnológico y el del desarrollo

las relaciones públicas el comercio internacional las finanzas e incluso las ciencias todas estas materias necesitan del conocimiento y las competencias en lengua inglesa para un desarrollo efectivo de la actividad y la vida misma nos va a exigir cada vez

sean marineros o no estamos plenamente de acuerdo en que se impartan materias íntegramente en inglés de hecho consideramos que es deseable y necesario

el análisis para la posterior implantación del inglés como lengua vehicular en esta y otras materias cuyo ejercicio profesional se desarrollen

en inglés consideramos que garantizar un verdadero conocimiento de la lengua inglesa que permita el correcto desarrollo de la actividad es totalmente necesario

y este es un asunto prioritario en un contexto como este en el que la búsqueda de empleo es cada vez más dura ciertamente la iniciativa del grupo socialista se refiere a los planes de estudio de los grados y másteres de la escuela superior de náutica diseñadas pueda haber planteado creo argumentos de peso como para no poder rechazar en absoluto la iniciativa que ha presentado

a esto de lo que he hablado pero nosotros hemos querido digamos ampliar el abanico temático por así decirlo para

observar más allá de lo que él planteaba pero en todo caso lo que el grupo socialista plantea nosotros estamos de acuerdo y votaremos a favor y también estaríamos dispuesto a votar a favor de la enmienda del grupo popular que me parece que también es

de educación a que realice un análisis pormenorizado y posteriormente un plan para integrar progresivamente la lengua inglesa

cuya profesión relacionada se desarrolle total o mayoritariamente

creo que esto es un objetivo al menos a medio plazo es un objetivo ambicioso y creo que deberíamos ya ponernos a pensar en ello nada más y gracias

hoy ha venido con el mantra de siempre que nosotros no queremos el inglés

los alumnos que se matriculan en náutica han desarrollado ya sus conocimientos en los dos idiomas oficiales euskera y castellano hori

legez bestekoan argi eta garbi azaltzen da eta beste alde batetik las salidas ligadas al mundo profesional de los alumnos de náutica tienen en el inglés

de reconocimiento de los estudios oficiales realizados en euskera y de exención de la acreditación con títulos y certificaciones lingüísticas en euskera nahiz eta

zure ekarpenean zer da esaten duzunean conocimiento sí lo más importante es el inglés

con fluidez en inglés bueno escribir también hablaría pero

orduan vamos a aclararnos de qué nivel de inglés tienen que conseguir estos alumnos y estas alumnas esa es la primera cuestión que usted

pero lo que sí está claro es que usted utiliza distintas varas de medir hau guztia dela eta

porque después de su intervención a pesar de que ponga cara de extraño usted y la señora celaá

que me da la impresión de que no sabe lo que quiere no no no no porque usted plantea en un principio el cien por ciento

luego habla de conocimiento sí de los contenidos de qué estamos hablando el ce uno vamos a ponernos de acuerdo en los acuerdos de qué estamos

es decir si no sabemos qué es lo que tenemos que conseguir es que no me extraña que usted

ahora cien por ciento ahora cincuenta por ciento y si puede ser cincuenta por ciento y un poquito más eso es lo que tenemos que aclarar por lo tanto

lo que planteamos y por eso hemos pactado con el partido nacionalista vasco es que sea la propia universidad la que mejor conoce la situación

ella misma la que haga el plan y lo incorpore en lo que es el plan

lo que nosotros planteamos pero esas cuestiones son previas es lo que hay que hablar es lo que hay que clarificar besterik ez eskerrik asko

batera heldu zaion kontu bat izanik pero mire la ley orgánica de universidades seis barra dos mil uno de veintiuno de diciembre en su artículo dos

sobre la autonomía universitaria dice en su punto número uno las universidades están dotadas de personalidad jurídica y desarrollan sus funciones en régimen de autonomía

dos en los términos de la presente ley la autonomía de las universidades comprende la elaboración y aprobación de planes de estudio e investigación y de

formación y promoción del personal docente e investigador y de administración y servicios así como la determinación de las condiciones en que han de desarrollar sus actividades tres la actividad de la universidad así como su autonomía se fundamentan en el principio académica que se manifiesta en las libertades de cátedra de investigación y de estudio y cuatro corresponde a cada comunidad autónoma las

erlazioei eman beharreko neurritasuna alde batean utzi egiten duela creemos que los órganos rectores de la upv nos responderían muy amablemente en este caso a la instancia que le hace el partido

y no a través de una pnl exigiendo en este caso no a la universidad sino al departamento algo así como nos podrían responder pues que están dispuestos aclarar

les planteásemos que agradecerían muchísimo nuestras sugerencias las aportaciones porque las aportaciones generan mucho valor y que seguro que la propia universidad seguro que la propia upv pues sabrá administrar e incorporar a sus debates internos con el objeto de poder mejorar sus procesos eso sería la respuesta razonable

el partido socialista se hubiese dirigido directamente a la universidad a informarse de cuáles son los motivos o las razones por las que se imparten las enseñanzas que el partido socialista pide que se imparta en inglés de la forma que se imparten

a la universidad que no que tampoco es de recibo

sí pudiendo ser de recibo no es de su competencia y si su aprobación hoy en este pleno dejaría en mal lugar todos los debates y pronunciamientos que tanto

la necesaria autonomía de la universidad del debate político más si cabe en cuanto a su organización interna y a temas concretos en este caso docentes

no décimos que no se pueda hablar de cómo poder mejorar la upv

organizan sus grados para cumplir ahí sí con la vocación que este parlamento le ha otorgado mediante ley orgánica parece quedar fuera de lugar en este caso el departamento de educación cómo no puede trabajar conjuntamente y así lo hace con la universidad para elaborar planes conjuntos como el plan universitario etcétera

que el grupo socialista trae hoy al debate pues se incorpore en sus propios planteamientos gure ustez logikatik kanpo gelditzen da ganbara honek

irakatsi behar den mucho más saludable como le he dicho antes sería pedir información a la propia universidad que nos expliquen realmente cuáles son los objetivos por qué determinados grados incorporan algunas asignaturas en inglés y otros no si es por razón operativa o por razón pedagógica o por una razón

en inglés y por qué no ampliarlo a otras carreras

vivimos en un mundo globalizado y quizás debería de solicitarse que en el resto de grados o en ciertos grados

se pueda cursar también en ingles

donde debe de ser implementado cuándo debe de ser implementado en el curso dos mil veintidós dos mil veintitrés en la proposición no de ley inicial y ayer usted adelantaba el plazo en la propuesta de transacción que nos pasaba

su cumplimiento para nosotros eso señor azkue no es de recibo hay que solicitar a la universidad y no al departamento de educación que no es competente en esta materia otra muestra que creemos que es del desconocimiento que se refleja en esta pnl viene referida a la ley que dicta

en las lenguas oficiales el euskera y el castellano y ustedes han incluido junto con los masteres también los grados oficiales mire para los masteres o postgrados no es necesario contar con acreditación profesional por parte de los profesores pero para los grados en cambio sí

hay un único profesor acreditado en estos momentos y sí que se imparten asignaturas en inglés pero no en el grado completo y una de las razones por las que no se imparte es

pero es que fuera de este debate está la realidad de la que usted o su grupo se han alejado que quiero entender que de forma involuntaria la universidad es

de asignaturas en inglés por tanto vuelvo a repetir no tiene efecto en este caso instar al departamento

garantizar que esa medida se vaya a llevar a cabo existe un plan universitario acordado universidad entre el gobierno y la universidad que recoge acciones para el impulso de la docencia en otros idiomas no oficiales entre los que se encuentran cómo no el idioma inglés

para dedicar esos fondos a distintos centros y en diferentes titulaciones el departamento de educación lo digo también por el segundo punto de la enmienda del grupo popular no es un órgano de contratación de profesorado universitario

no oficiales no es un requisito sino un mérito voluntario por tanto no puede asegurarse que se incrementen el número de profesores acreditados por ley repito debemos ofrecer los grados en su parte troncal y obligatoria en ambos

no es una opción con la legislación vigente y mucho menos marcarle a la propia universidad

la defensa de la autonomía universitaria la existencia de un plan de plurilingüismo en la propia universidad

y el plan universitario acordado entre el gobierno y la universidad que incluye partidas específicas para la impartición en idiomas no oficiales deberían ser

como para que el interés del partido socialista se hubiera convertido no en una proposición no de ley instando al departamento sino en una consulta la propia

una cuestión es que cómo a una política

o se le discute con la burocracia con lo burocrático con lo existente la ley hay

es donde se decide cambiarlas hacerlas o lo que sea

y después recordarme que la autonomía universitaria

yo he estudiado en la escuela de náutica de portugalete y antes de venir aquí

estado solo con el foro marítimo

he estado con los propios profesores de la escuela de náutica de portugalete

que las iniciativas normalmente que presentamos los socialistas están basadas en suelo

en el aíre no y eso es lo que hemos hecho trasladar precisamente lo que hemos hablado a leire le voy a decir qué es lo que me dijo por primera vez

es que la ley nos impide porque en la ley dice

castellano y euskera bueno pues cambiamos la ley porque estáis

en donde corresponde legebiltzar honetan oiga qué oportunidad

y no seguir no haciendo no sé por qué juanjo yo la verdad debería de discutir usted

a los que nos quejamos en la ponencia de la margen izquierda que oiga mire

es decir para que se nos dé también a los de aquí algo que es

pues esas clases de inglés para que realmente seamos capaces de traducir exclusivamente a los programas que nuestros gobiernos sean forales o desde lakua hacen para los ciudadanos

esa es la realidad de la sociedad no le demos muchas vueltas porque internet no se corta

y se actúa y nuestros chichos y nuestros niños actúan en inglés desde esa edad y nuestra

y no atrás y decir lo que nos viene qué es lo que vamos hacer me recuerda aquel que

no se preocupe esa opinión es de derechas nosotros pararemos la globalización no van a parar el inglés nadie entonces si creemos y queremos construir una sociedad vasca demos oportunidad

y además más en una sociedad que ustedes mismos y yo también reclamamos que los puestos de trabajo que vamos a ocupar van a estar muchísimo más ligados a la modernidad tecnológica y a la realidad de una industria distinta diferente tecnológica avanzada etcétera y eso significa pensar en inglés

internacionalizar nuestra universidad es otra obligación que tenemos pero no quiero irme demasiado a una discusión súper global porque quiero limitarme de nuevo

sin ningún ánimo juanjo sin ningún ánimo de comparar de no sé qué intenciones de qué he hecho dos versiones

sus dos primeros años de carrera las imparten en el idioma de ese país

la de ayer la propuesta que les hice ayer y los dos últimos años cuando están ya próximos a la salida profesional la hacen en inglés exclusivamente en

van los niños de los que podemos mandar a los niños porque mi hijo sí lo reconozco delante de ustedes hizo

perfectamente castellano y perfectamente inglés pero es

es de clase media y puede hacerlo otros no no les quitemos esa oportunidad en la náutica a los que no pueden hacer como yo demos también esa oportunidad porque si no estamos discriminando pero termino

nadie puede negar cuáles son las salidas de nuestros hijos cuando adoptan la carrera de náutica

anunciar que votaremos a favor de la propuesta socialista porque nos parece

dejar las cosas como están y no hacer nada creo que efectivamente estamos aquí necesitados de

que tiene que afrontar de una manera mucho más decidida la apuesta por el inglés y creo que es algo que no está haciendo a tiempo

azkue jauna dos cuestiones dos tres cuestiones porque al principio

ha intentado copiar el discurso del partido popular diciendo que nosotros lo que queremos es parar el inglés no es así no es cierto yo lo que lo he dicho es que efectivamente usted me lleva millas en esto de la náutica y en

lo que le he dicho en mi primera parte lehenengo zatian esan dizudana da

euzko alderdi jeltzalea siempre ha apostado por el trilingüismo

otros grupos también de esta cámara durante muchos años hemos defendido y seguiremos defendiendo el trilingüismo otra cosa es que además de esa defensa

a organizarse dos cosas dos defensas totalmente compatibles entre ellas

de la propuesta lo podemos comentar cómo no pero venir a esta sede parlamentaria con una exigencia pidiendo el departamento no a la universidad pervirtiendo encima

y de ahí a nuestro grupo no nos van a sacar preguntemos por lo tanto a la propia universidad como le he dicho acepte esa oferta que le he hecho en mi anterior intervención preguntémosle

esa situación y claro que me parece estupendo y perfecto que usted haya investigado como nos ha dicho aquí en esta

pero entonces por qué lo plantea como una exigencia por qué quiere saltarse esa autonomía universitaria que está

también ha dicho que si hay que saltarse las leyes usted vendrá y propondrá esa modificación de las leyes hasta ahora

lo haya hecho pero creo que con las actuales leyes vigentes no podemos hacer lo que usted nos plantea no negamos la necesidad del inglés claro que no cámara llevamos muchos años dando pasos hacía el plurilingüismo pero vuelvo a repetir choca totalmente con la autonomía universitaria la universidad es tremendamente accesible le vuelvo a repetir a recibir consultas de este parlamento de cada uno de estos grupos parlamentarios por lo tanto usted reciba como positivo ese ofrecimiento y dirijámonos a la universidad no exigiendo al departamento que haga cosas

y defendemos cómo no vuelvo a repetir una y mil veces con la misma vehemencia que usted lo ha defendido hoy aquí el trilingüismo no se equivoquen y no quieran tergiversar cuál es la postura de este grupo

y entendemos cuáles pueden ser las razones de su proposición

incluyen asignaturas en inglés pero quizá deba ser la propia escuela náutica de ingenieros o la propia universidad quienes deban de marcar los tiempos en cuanto

el plurilingüismo ver también cómo entran los propios alumnos a la universidad con qué capacitación entran en la universidad la necesidad de tener que adaptar el profesorado a esa tendencia de alumnos y de alumnas competentes en tres idiomas antes no me he referido pero sí que lo voy a hacer ahora en mi anterior intervención

creo que son importantes de recordar algunas de las palabras de su compañera celaá cuando era consejera incluso cuando

oposición isabel celaá a través de el artículo de el país el siete de marzo de dos mil cuatro que se titulaba a dónde llevan la upv es decir

a modo de la academia platónica como un espacio o lugar con lógica ajena e independiente al control político señor azkue

inicial se convierte la upv en un espacio o lugar independiente al control político el catorce de mayo del año dos mil nueve también estrenada en este caso la señora celaá como consejera decía y recogía la agencia celaá y el rector se comprometen a trabajar con lealtad

celaá ha subrayado que su departamento cree firmemente en la autonomía que tiene la universidad y ha abogado por trabajar desde la lealtad para abordar unas relaciones interinstitucionales de alta calidad le pregunto señor azkue con esta pnl que usted pretendía aprobar hoy en este parlamento se mejoraría esa lealtad que citaba la señora celaá

creemos tenemos la percepción de que la buena voluntad de mejorar que seguro está detrás de esa iniciativa de esa proposición no de ley suya

universidad que en buena medida y por ley orgánica es diferente a la educación

pero es que aún así fíjese he sacado otra de las frases

que con esta proposición también hecha usted por la borda el objetivo es decía la señora celaá avanzar hacía ese trilingüismo adhesión donde los centros en función de sus recursos humanos del área sociolingüística y de sus proyectos modulen las proporciones de una lengua y otra nos parece perfectísimo puesto que antes y después del paso de la señora celaá por el departamento también se trabaja por la autonomía
de los centros amaitzen joan corrales anderea no es algo que promueva un partido político

en euskadi se ha abogado siempre por la autonomía de los centros en la enseñanza y mediante la ley orgánica en el caso de las universidades le animo por lo tanto
en este caso eskerrik asko señor azkue al partido socialista a corregir su postura y a apoyar nuestra enmienda

abogamos porque se analice dentro del propio plan de plurilingüismo de la universidad sus competencias lingüísticas y la adquisición de esas competencias lingüísticas que nosotros décimos

esas opciones de mejora eskerrik asko amaitu eztabaida amaituta bai